desde eh bildu hemos hablado de soberanismo social y así es nuestro soberanismo es fundamentalmente social porque parte de las necesidades

y porque su fin es la construcción colectiva de un país nuevo un país diferente donde todas las personas que lo habitan

y en justicia social porque vivir no es lo mismo que habitar

un país donde todas las personas que viven en el realmente puedan vivir con plenitud donde desde un punto de vista tanto económico

y cultural queremos poner la vida en el centro de la agenda política y aspiramos también para ello a un reparto justo de la riqueza que entre todos y todas generamos queremos el poder de decisión todo el poder de decisión y lo queremos

para los ciudadanos y para las ciudadanas para que nuestro país en justicia social atendiendo y satisfaciendo las necesidades de las personas que están en la peor de las situaciones en la situación más difícil y eso tiene que suceder a costa de suprimir democráticamente los privilegios de las élites económicas y financieras que se han atrincherado en las decisiones políticas que se toman en madrid en parías y en bruselas

el santander deciden la dirección económica las directrices económicas del estado español

y con eso deciden todos los vaivenes de las principales condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas

demokrazia demokrazia formala azken urteetan hustu egin da la democracia representativa es cada vez más una carcasa

vacía de contenido real utzik dagoen oskola bat porque las decisiones

las decisiones fundamentales las que condicionan al resto se toman en otra parte herritarrak ordezkatzen dituzten instituzioetan gero

la democracia la de verdad la de hacer política por y para la gente y porqué no

está secuestrada por una élite financiera que no sabe ni de fronteras ni de escrúpulos éticos esa es la situación real a la que nos enfrentamos nuestras instituciones deciden dentro de los estrechos márgenes les ponen ayer mismo escuchamos a pedro sánchez decir que todo el mundo tranquilo que están dispuestos a cumplir todo lo que les digan y están dispuestos a respetar

que otros deciden por nosotros y por nosotras y consecuencia de esos márgenes son la última reforma laboral el repago farmacéutico

y la pérdida progresiva de calidad de nuestros sistemas públicos de sanidad y de educación pese a los increíbles esfuerzos de los trabajadores y las trabajadoras de los mismos por obtener parecidos resultados con muchísimos menos recursos

o por lo menos una parte de la misma halaber

europa no es solo un movimiento es un conjunto de características comunes presentes en cada vez más numerosos e influyentes movimientos sociales de todo el continente a los abusos de los poderosos frente a un poder cada vez más lejano e inaccesible

hacia la democracia representativa a la que se le acusa de simple testaferro de esos poderes económicos y financieros

apuesta por modelos de democracia directa como única vía posible de retorno al significado original del concepto democracia

quiere decidir quiere decidir porque se siente políticamente mayor de edad y no necesita que nadie le lleve de la mano a ninguna parte

y quiere también decidir sobre cuestiones pequeñas pero que para ella resultan fundamentales cuestiones que tienen que ver

con el centro de salud del barrio con la infraestructura cultural o deportiva que tiene prevista el ayuntamiento con el fracking con las condiciones laborales de su empresa o

son autoritarios les gusta mandar a ellos hay quienes lo ven positivo pero dentro de un orden porque consideran

cuando decide cada cuatro años que ellos se sienten en los asientos

y hay quien pese a las dificultades y la complejidad que acarrea tratar de compatibilizar la democracia representativa con fórmulas de democracia directa consideran

a la democracia real democracia que es en si misma una herramienta de transformación social o debería de serlo porque empodera a la sociedad es decir le da poder de decisión la hace soberana de sus propias vidas qué menos se puede pedir en este siglo veintiuno lo hemos dicho en numerosas ocasiones una sociedad que se acostumbra con normalidad a decidir a tomar sus propias decisiones y pequeñas sobre cuestiones cotidianas y también sobre cuestiones transcendentes

democráticamente mucho más madura socialmente mucho mas cohesionada y mucho más hábil y tolerante a la hora de gestionar su propia complejidad

eta gehien garatu duen mugimendua en esta sociedad en la que vivimos tan de vuelta de todo las mujeres continúan siendo sujetos pasivos

que siguen viendo en ellas única y exclusivamente objetos a los que utilizar y objetos que maltratar y desechar cuando no son útiles para sus intereses

que son sujetos activos y van ha ser las únicas dueñas de sus vidas y también tienen claro que si en su proceso de empoderamiento

por mucha que sea su fuerza por muy grande que sea su capacidad de hacer daño y esas mujeres han hecho de su proceso de empoderamiento personal un proceso de empoderamiento colectivo el de toda una sociedad

contra la violencia machista y lo que es más importante contra el modelo social

o por lo menos así debería de ser es en homenaje a esas mujeres que nuestro proyecto de ley se llama de empoderamiento porque queremos una sociedad

soberanas amos y amas de su destino capitanes y capitanas de su alma

y tres para buscar acuerdos para buscar acuerdos aquí con quien sea receptivo con quien sea receptiva a la idea

el derecho a decidir que nos corresponde fuera de aquí con los grupos políticos que a día de hoy no están aquí pero que dicen estar

y también cómo no con todas las fuerzas sociales con el movimiento social y con los sindicatos y con toda la sociedad civil organizada que entendemos que tiene que ser parte fundamental de este proceso un proceso

y que tiene que acabar con el empoderamiento de nuestra sociedad y con la materialización del derecho a decidir hori da gure helburua bidea

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos comencemos a desmontar la demagogia barata realizada por el señor arraiz

esta ley ha querido ser denominada por parte de eh bildu como ley para el empoderamiento aunque más bien tendría que haberse llamado en nuestra opinión

lo que básicamente propone es que haya una parte de la ciudadanía que no pueda tomar sus propias decisiones y realmente es esto lo que pretende esta iniciativa no es dar más poder a la gente sino quitárselo no es dar más poder a los ciudadanos vascos sino

al resto de los ciudadanos españoles para que no puedan decidir en relación a asuntos sensibles que les afectan

por lo tanto esto es lo que pretende eh bildu con su iniciativa que los restantes ciudadanos españoles no tengan voz ni voto a la hora de decidir

de la constitución española y que finalmente se plieguen y nos pleguemos todos a los postulados

meridianamente claro en el momento en que registro esta iniciativa dijo que

de la negación y de la imposición esta es nuestra respuesta cuando realmente no hay mayor ejercicio de imposición

como la que se nos ha planteado lo dijo el señor arraiz entraremos en un escenario de confrontación política preparados para ello y añadió que solo vamos a obedecer al mandato de la ciudadanía vasca y no obedecemos a lo que madrid pueda pensar por lo tanto

se reivindica el derecho a decidir por parte de eh bildu pero lo que realmente pretenden los nacionalistas no es ejercer ese derecho

se pretende es impedir que los restantes ciudadanos puedan también decidir lo que a todos afecta el señor arraiz decía en su intervención

en realidad lo que se está diciendo es que se quiere quitar ese poder

ciudadanos de este país por lo tanto lo que se pretende es impedir que los restantes ciudadanos puedan también decidir lo que a todos afecta no pretende quitar poder a repsol a los poderes económicos o financieros

o a los poderosos sino que lo que pretende es quitar poder y derecho a decidir y poder decidir a los restantes ciudadanos españoles porque

sí existe en él se basa todas las democracias de nuestro entorno

y en el ámbito de sus competencias su propio futuro y las decisiones que directamente les afectan lo que eh bildu nos propone es una idea profundamente reaccionaria se pretende fraccionar ese derecho a decidir se pretende romper españa y se pretende

todos los ciudadanos españoles lo que eh bildu nos propone en el fondo más allá de demagogias baratas es levantar fronteras entre conciudadanos reducir nuestro espacio de convivencia y recortar por lo tanto

decisiones además lo que eh bildu nos propone es vulnerar

e incumplir la propia constitución marco legal que puede cambiarse pero que de querer cambiarse debe cambiarse a través de los cauces legales establecidos

de esta proposición de ley por todas estas razones por ser inconstitucional profundamente antidemocrática y reaccionaria el gobierno vasco en su acuerdo de manifestación de criterio en relación a esta iniciativa señala que no se opone a ella no se opone obviando la pretensión cierta y real de eh bildu

el inexistente derecho a la autodeterminación contra la legalidad

la ciudadanía compartida motivo por el cual podemos concluir otra vez que nos encontramos ante una nueva muestra de cobardía intelectual

del partido nacionalista vasco porque más allá de lo que se diga en esa iniciativa eh bildu no pretende profundizar en la democracia sino saltársela eh bildu no pretende que los vascos ejerzamos nuestros derechos

sino impedir que los restantes ciudadanos puedan ejercer lo que les corresponde eh bildu plantea una vía para que la sociedad vasca tenga capacidad para decidir cuestiones políticas sociales

sin embargo no propone eso o no garantiza eso sino que impidamos

a codecidirlas en función de las competencias hoy vigentes y que comparten su ciudadanía con nosotros no puedan hacerlo y desde luego no nos corresponde como

nuestra capacidad de decisión sino exclusivamente en aquello en lo que tenemos competencias y en base a la legalidad vigente porque del mismo modo que la ciudad de san sebastián mañana no puede tomar

tampoco euskadi puede tomarlas de espaldas o contra el resto de españa no puede hacerlo se trata sencillamente de cumplir la legalidad vigente y bien sabemos que sin ley no hay democracia

de manera demagógica contarnos milongas o cuentos y desde luego democracia también implica y obliga a impedir

muchos decida él solo y contra los restantes conciudadanos y esto no lo impone madrid la democracia se trata como digo de salvaguardar las normas legales la constitución española y la propia democracia lo que ocurre es que efectivamente

pueda decidir entre otras cosas porque consideran que únicamente ellos son

ciudadanos es por tanto una iniciativa profundamente

por mucho que se pretenda edulcorar o mezclar tramposamente esta iniciativa con conceptos como participación profundización democrática o transparencia por mucho que el señor arraiz haya hablado hoy aquí de en fin de feminismo o de justicia social de desigualdades sociales o genéricamente lo que pretende es privar a una parte de la ciudadanía de sus derechos este es el resumen fundamental no solamente del nacionalismo sino también en concreto de esta iniciativa ante este propósito lo que el gobierno vasco debería haber hecho es haber mostrado su criterio

a esta iniciativa y lo que debería hacer hoy el partido nacionalista vasco es votar en contra y si el pnv no vota en contra de esta iniciativa estará diciendo que

también están dispuestos a saltarse la ley cuando lo consideren apropiado y esto es extraordinariamente grave

vasco en este caso vaya a votar o el partido nacionalista vasco a favor de una iniciativa que pretende romper la ciudadanía compartida y saltarse la legalidad vigente en fin todo esto digamos que no son opiniones de upyd

a defender son simples conceptos básicos en los que se basa cualquier sistema democrático y desde luego la democracia representativa la ciudadanía

la soberanía en nuestro caso corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles el derecho a la autodeterminación no existe en ninguna constitución democrática del mundo salvo entendido como lo he explicado yo es decir el derecho de los ciudadanos a participar

que les afectan bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del estado ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la constitución excluyendo al resto de dicha decisión ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio de los derechos y libertades que la constitución

de los ciudadanos españoles y esto es lo que pretende esta iniciativa como digo estos son simples conceptos básicos en los que se basa el sistema democrático

ideas de upyd he puesto encima de la mesa lo que son principios básicos en los que se fundamenta cualquier sistema democrático en conclusión votamos no porque la propuesta no solo es profundamente antidemocrática y claramente ilegal

sino profundamente absurda en el mundo globalizado

y en la europa de ciudadanos libres que queremos

motivos uno de naturaleza de dimensión jurídica y otro de naturaleza política

para el grupo proponente sean los menos importantes tenemos que decir que el texto de la proposición de ley que hoy se somete a votación es un corta y pega es un corta y pega

prácticamente literal de la ley diez barra dos mil catorce de veintiséis de diciembre de consultas populares no refrendarias

de participación ciudadana de cataluña

que una de las dos patas que tienen estaba en cataluña lo que da la sensación después de escucharle también y sobre todo teniendo oportunidad de conocer el texto es que tienen las dos piernas en cataluña la proposición de ley que se plantea se presenta el treinta de noviembre del año dos mil quince

nueve meses después de que fuera declarada la inconstitucionalidad de varios preceptos de la ley catalana de referencia

y que no obstante a pesar de haber sido declarados de inconstitucionalidad

tal cual en el texto de la proposición de ley la sentencia del tribunal constitucional insisto aunque a una parte de esta cámara no le interese no le importe o no le condicione creemos que es bueno traerla a colación la sentencia del tribunal constitucional del veinticinco de febrero de dos mil quince declaró inconstitucionales

este que habla de las consultas populares no refrendarías que pueden ser de carácter general o sectorial las

y también declaró inconstitucionales los apartados cuatro punto nueve del artículo

dichas frases son textual y sistemáticamente mantenidas de la misma forma y en el mismo artículo

objeto de votación al igual que persiste también en sostener la literalidad de los apartados en el mismo artículo y en los mismos párrafos participa en consecuencia esta proposición de la inconstitucionalidad declarada en cuanto a la ley catalana

en una evidente burla a la resolución del tribunal constitucional que a nosotros

y un palmario desprecio a la legalidad que a nosotros sí nos importa pero esta iniciativa no solamente resulta inconstitucional en cuanto a las consultas generales sino

en lo relativo a todas las populares reguladas en el artículo dos con carácter competencial

la proposición de ley regula en todo el título segundo bajo la denominación de consultas generales una verdadera consulta refrendaria articulada como llamamiento al cuerpo electoral a través

las consultas sectoriales reguladas en la proposición de ley literal copia insisto como todo el texto de la ley catalana

más restringido que el cuerpo electoral en cuanto articulan voluntades particulares o colectivas pero no generales esto es no imputables al cuerpo

estas consultas sectoriales son cauces de participación cuya regulación por el parlamento vasco no resulta posible por cuanto carecen del imprescindible título competencial estatutario a diferencia

del texto catalán que contaba con esta cobertura en el artículo ciento veintidós de su estatuto por lo tanto esta proposición de ley no solo ignora la constitución española sino también nuestro propio estatuto de autonomía lo cual insisto como decía al principio no sorprende viniendo de bildu aunque algo más sí sorprende

aunque quizás no demasiado pero decía que además de los argumentos jurídicos también existen argumentos de carácter político

son igual de rotundos esta iniciativa

persigue dotar de herramientas para conseguir la independencia de euskal herria si somos claros es esto lo que ustedes pretenden y este es el objetivo

en procesos de participación sino de profundizar en el objetivo político independentista modelos fracasados social y políticamente

a euskadi lo que se ha demostrado con el tiempo como un ataque directo a la convivencia y al entendimiento se pretende ahora reproducir tal cual en euskadi y bildu nos quiere equiparar a cataluña pero nosotros queremos como vascos nosotros defendemos que la democracia representativa debe de seguir modernizando las herramientas de las que se dota para prestar un mejor servicio al ciudadano que debemos de seguir profundizando en políticas de participación

que los gobiernos e instituciones deben de dotarse de más y mejores medios de conexión con los ciudadanos pero no vamos a participar ni favorecer una estrategia política que pretende conseguir un objetivo obviamente político

que además de nocivo en lo económico y lo social provocaría un deterioro de la convivencia y entendimiento entre vascos sorprende o no yo les tengo que confesar que a mí todavía estas cosas me siguen sorprendiendo

sorprende insisto o no que el gobierno vasco no se oponga en su criterio a la tramitación de esta iniciativa insisto manifiestamente inconstitucional

sobre consultas populares cuando hace tan solo seis meses fue el propio gobierno vasco el que vetó el que se opuso a la tramitación de una iniciativa legislativa popular

esta de la garantía de ingresos y para la inclusión social que fue avalada por más

firmas de vascos y de vascas y en este sentido

por haber arrastrado al gobierno vasco y probablemente ahora lo veremos al partido nacionalista vasco por haber arrastrado

estrategia a todo el gobierno vasco y al partido nacionalista vasco y para terminar una cuestión menor el señor arraiz se refería ha dicho literalmente

esto es un discurso y a bildu la utilización

es un discurso muy podemos allá ustedes en sus urgencias cómo quieran combatir sus urgencias electorales pero la gente son ciudadanos es que vivimos en un estado democrático social y de derecho

son ciudadanos con derechos y obligaciones sí son ciudadanos

tenemos poder a diferencia de su discurso que parece que quieren alumbrar la democracia y otorgar el poder a la gente los ciudadanos en euskadi afortunadamente sin necesidad de que bildu no lo otorgue tenemos poder y hemos decidido nuestro pasado

y seguiremos defendiendo nuestro futuro otra cosa es que a ustedes no les guste los ciudadanos vascos otra cosa es que ustedes quieran por la puerta de atrás

quieran alterar esa decisión insisto en el pasado en el presente y la que seguiremos tomando los vascos

cuestionando el sistema democrático del que nos dotamos hace ya más de treinta años y cuyos beneficios para la sociedad vasca son más que evidentes es legítimo que ustedes no compartan el sistema es legítimo que ustedes tengan un proyecto alternativo

es que nieguen la democracia en euskadi que nieguen que los vascos somos ciudadanos y que nos releguen a gente que nieguen

acertadas que nieguen la legitimidad de los procesos democráticos y de las consultas electorales que se han producido en euskadi en toda la democracia eso no es legítimo porque para defender una posición política no se puede negar la legitimidad que hemos tenido que tenemos y que tendremos los vascos

como lo que venimos haciendo en toda la democracia es legítimo que a ustedes no les guste el equilibrio no les guste la democracia representativa
ni sus sucesivos resultados amaitu sémper jauna

como es legítimo también que nosotros que probablemente no mayoritariamente hoy pero que nosotros no estemos dispuestos a entrar en ese juego que insisto no quiere profundizar en modelos de democracia

particular que es la independencia de euskadi muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

dos parlamentarios que han hablado antes que yo he de reconocerle que yo estoy contento de lo que he oído

me ha parecido interesante que usted haya sido capaz de encontrar la fórmula mágica que soluciona de un plumazo los problemas políticos sociales económicos financieros e incluso de relaciones personales

porque nos hubiera ahorrado un esfuerzo legislativo enorme en esta cámara

hubiéramos solucionado con esta ley todos los problemas que afectan a los vascos para muchos años pero el problema es que no es así como usted lo ha contado porque todos sabemos y ustedes mejor que nadie

estéril y falso estéril porque somos conscientes y ustedes también

traducido ley de consultas no tiene posibilidad alguna y ustedes lo saben en lo poco que queda de legislatura de llevar a buen puerto

pero también porque su pretensión principal a la que me referiré ahora excede de forma abierta y manifiesta a las competencias de esta cámara y sobre ello

muy precisos y además dos sentencias determinantes y lo que ya me parece el colmo de la desvergüenza es que usted empiece a justificar esta ley

porque nosotros en lugar de traer esto que es un entretenimiento lo que hemos hecho es promover una declaración institucional para apoyar la continuidad de la empresa todo lo demás son oropeles oropeles y es un debate falso porque todos sabemos que a pesar de que se invoquen principios tan encomiables

el empoderamiento o la política abierta lo que se pretende de verdad con la proposición es colar la famosa consulta no las consultas ciudadanas perfectamente factibles en distintos ámbitos y materias por ejemplo sobre la forma de reciclar las basuras en una localidad

sobre la instalación de una planta de energía eléctrica en su municipio

sobre algo que les afectaba directamente y en el segundo caso con la central eléctrica de boroa tampoco parece que el pnv estaba muy dispuesto a que eso se celebrase y además el pnv puso encima de la mesa tres razones para negarla

segundo que excedía el ámbito competencial y tercero que dividía a la ciudadanía fíjese usted los mismos argumentos que usamos los que defendemos que una ley de consultas no consigue solucionar nada sino empeorar los problemas en fin la única consulta que a ustedes les pone y les interesa de verdad

nuestro grupo va a votar en contra de la proposición de ley de bildu no porque seamos contrarios que no lo somos a que se consulte a la ciudadanía en asuntos controvertidos

y participe y decida en asuntos públicos pero sí reclamamos que esto se haga sin trampas y siguiendo los procedimientos establecidos por eso nos opusimos en la mesa

porque así se actuó en mil novecientos noventa y ocho sobre la base de un informe jurídico del letrado mayor de este parlamento ante una propuesta para celebrar una consulta sobre la independencia

lo que dice ese informe del parlamento vasco es lo mismo por cierto que ha dicho el tribunal constitucional

que el tripartito de ibarretxe aprobó en el dos mil ocho y sobre la ley de consulta catalana hace ahora un año resumiendo

no deja de ser a todos los efectos un referendum regulado en el artículo noventa y dos de la constitución y según establece

la autorización para convocar una consulta de este tipo es competencia exclusiva del estado y eso ya sin entrar a considerar cuál vaya a ser el objeto de dicha consulta

en consecuencia mientras no se cambie la constitución la regulación por este parlamento de consultas de esa naturaleza está fuera de sus competencias y usted lo sabe perfectamente señor arraiz y también lo saben los señores del pnv

aquí no estamos hablando ni de cuestiones jurídicas ni de participación ciudadana sino de pura política pero de política partidista

de la pugna que ustedes tienen entabladas con el pnv por la hegemonía del mundo nacionalista puro oportunismo para intentar poner en un aprieto al señor urkullu y al señor egibar y a ver si consiguen ponerles

como el pnv enterró la previsión que había hecho en su programa electoral por cierto de someter en el dos mil quince este año que hemos pasado ya a refrendo popular el nuevo estatus que pretende

a las urnas a las calles de euskadi en el dos mil dieciséis para eso anunció la presentación de una ley de consultas el pasado ocho de septiembre en vísperas de la diada

y como tanto le motiva el proceso constituyente que por cierto tiene empantanada a cataluña desde hace años

literalmente el contenido de la ley de consultas no refrendarias aprobadas por el parlamento catalán y anulada parcialmente por el tribunal constitucional

no debió ser admitida a trámite y no debiera ser ahora tomada en consideración por ser una mala copia de la ley catalana tan mala que se limitaron a sustituir el enunciado del título poniendo ese tan rimbombante del empoderamiento de la ciudadanía que le sirve a usted para hacer un discurso feminista a quitar lo de no refrendarias de la palabra consulta

de la legalidad algo que al menos intentaron los independentistas catalanes

por lehendakari euskadi y diputaciones forales si es que en el texto que colgaron en su página web ni siquiera pasaron el corrector

la frase los altos cargos de las instituciones catalanas que figura en el original transcrito fíjese hasta en la página del rincón del vago

antes de fusilar un texto que lo que han hecho ustedes y con este pleno afrontamos la recta final de la legislatura

que en euskadi y fuera de euskadi se esfuerza para superar los estragos de esta crisis que todavía tenemos encima y para la que no es la solución

iniciativas para ayudar a remontar la situación no sino lo de siempre buscando desbordar al pnv o al menos enredarlo con las obsesiones que comparten pues bien

va a ser evidentemente contrario a la toma en consideración de este proyecto de ley eskerrik asko pastor jauna

ser considerado gente yo por lo menos me encanta ser gente no tengo ningún problema

o a veces intentamos ser ciudadanos y ciudadanas pero lo que también tenemos clarísimo es que sus políticas económicas las políticas económicas que ha desarrollado el partido popular como testaferro de otros poderes económicos y financieros no nos ha tratado como personas

no le han tratado como personas con sus derechos básicos y eso es verdaderamente grave y está muy bien que ustedes traigan declaraciones institucionales

después de privatizar el que traigan declaraciones institucionales está muy bien si ustedes se quedan contentos con eso perfecto pero eso sí que es realmente inútil para toda esa gente que está sufriendo las consecuencias

y le voy a reconocer le voy a reconocer al partido socialista que han dado un paso adelante han decidido que por lo menos van a consultar a su militancia

están dando ustedes pasos también internamente aunque a idoia mendia no parece que le gustara demasiado porque dos días antes dijo que ellos no eran un partido asambleario

aunque luego dos días después ya le parecía mejor cuando lo anunció pedro sánchez es un paso adelante

pero por lo menos a los suyos van a empezar a preguntarles ez dago batere gaizki guk herritar guztiei galdetu nahi diegu herritar guztiei a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas

libremente o su única decisión se tiene que limitar a elegir a sus representantes cada cuatro años en nuestra opinión no

con vías de democracia directa que no hacen más que enriquecer y dotar de contenido

si es que realmente queremos democracia o si no aceptamos el chantaje y estamos dispuestos a ser simples testaferros

sí gracias ya digo la demagogia de toda la vida porque esos problemas que apunta el señor arraiz se resuelve a través de los procedimientos legales establecidos

a través de la presentación de enmiendas a través de los debates entre los grupos políticos es así como se solucionan esa serie de problemas las desigualdades sociales el machismo o la violencia de género o machista el paro la precariedad

financieros o mediáticos para solucionar todo eso existen los parlamentos y existe el debate entre fuerzas políticas que piensan diferente esto que ustedes plantean no pretende resolver nada de eso no pretende consultar

sino lo que básicamente pretende es que haya determinados ciudadanos que no puedan decidir que no puedan codecidir que no puedan opinar en relación a asuntos que evidentemente le afectan directamente como puede ser el modelo territorial del estado la constitución española o el futuro del país de españa por lo tanto el objetivo de esa propuesta no es solucionar nada de eso nada de eso resolvería al revés

coartar nuestras libertades coartar nuestros derechos y coartar nuestro derecho a decidir porque efectivamente

y queremos seguir ejerciéndolo pero evidentemente en base a las competencias de las que disfrutamos y respetando en todo caso la legalidad vigente y evidentemente seguimos defendiendo la democracia la constitución y la democracia representativa que es la base de nuestras libertades y lo que ustedes proponen ya digo no es ejercer el derecho sino que lo que ustedes proponen es que haya una parte de la ciudadanía que no pueda ejercer su derecho a decidir esa es la clave fundamental

en general nacionalista y en concreto en este caso de lo planteado por eh bildu pero seguramente sea más grave la posición del lehendakari y la posición del gobierno vasco seguramente lo más grave sea la cobardía del lehendakari y del gobierno vasco al emitir en ese documento elaborado por el propio gobierno su posición en relación a esta iniciativa ustedes no pueden decir que no se oponen a que esta iniciativa pueda debatirse

ilegal inconstitucional que lo único que pretende es avanzar en la desconexión de euskadi con respecto a españa es inconstitucional y es ilegal por lo tanto cualquier gobierno autonómico también democrático

esto es ilegal y por lo tanto tendría que haber mostrado su criterio desfavorable y esto es seguramente lo más vergonzoso del debate

puedan llegar a votar a favor de esta iniciativa una iniciativa ilegal

vulnerar todos los ciudadanos la legalidad vigente o únicamente puede pretender hacerlo el partido nacionalista y el gobierno vasco sin duda

y el partido nacionalista vasco y otra vez el partido nacionalista vasco se deja arrastrar en este caso evidentemente voluntariamente por las tesis más radicales

lo más grave lo más vergonzoso del debate de hoy que el partido nacionalista vasco vaya a dar a una iniciativa profundamente reaccionaría antidemocrática y claramente ilegal por lo tanto

sí les escuchamos lo que sucede es que no tenemos porque aceptar su interesado guion

no tenemos un problema ni auditivo ni de comprensión oral lo que sucede

otros ya se lo aceptan pero el resto no tenemos por qué hacerlo miren

desde el origen porque yo creo que ustedes no respetan la voluntad popular y le voy a poner dos ejemplos uno muy grave y otro importante

durante más de treinta años la inmensa mayoría de vascos una mayoría aplastante de ciudadanos vascos

queríamos poder dirimir nuestras diferencias políticamente exclusivamente con herramientas políticas y ustedes no aceptaron la voluntad popular de los vascos

durante más de treinta años vascos y vascas que queríamos de una manera contundente e indubitada que en esta tierra

que es lo mismo que decir que en esta tierra eta no existiera y no matara

la voluntad popular porque tienen todavía un trecho muy largo que recorrer

de espaldas a la voluntad popular expresada mayoritariamente insisto durante más de treinta años por los ciudadanos vascos y por las ciudadanas vascas

la demostración grave vamos con la importante pero que menos grave obviamente

un territorio histórico en el que existían muchos debates pero había uno también que no admitía duda sobre la voluntad mayoritaria de los guipuzcoanos que era en torno al tratamiento de las basuras

esa aceptación de herramientas de participación ciudadana no lo han hecho porque pueblos de gipuzkoa en particular y gipuzkoa en general fue se le negó la posibilidad a los guipuzcoanos de manifestarse sobre una materia sectorial o sea oportunidad que ustedes tienen

o voluntad que desprecian y rechazan estamos hablando de otra cosa y una cuestión no menor cuando usted

se nos acusa de cosas extraordinariamente extravagantes nos ha dicho que somos la voluntad del estado no señor arraiz sí usted ha venido a decir que somos representantes de un estado que niega

ciudadanos vascos gente pero también ciudadanos vascos somos gente

para euskadi sabe y creemos que lo que ustedes plantean es malo para los ciudadanos vascos para euskadi y por lo tanto nos oponemos no estamos de acuerdo con ustedes no aceptamos su guion ni el contenido de su guion no acepto que nos tache como representantes de no sé qué somos representantes de vascos y de vascas que nos han votado para que les representemos aquí

euskadi no solo en función de los que nos han votado sino de todos

homogeneidad la pluralidad de esta sociedad de tal manera que creemos que someterla
a una votación de un sí o un no es malo para euskadi amaitzen joan sémper jauna que someter a los vascos a una tensión

que les obligue a decidir si quieren a o b no es bueno para euskadi porque es imposible solución para una sociedad tan heterogénea tan plural que debe de buscar

nosotros lo que más nos ha sorprendido es la actitud del gobierno vasco

política de bildu y nos sorprende también que el partido nacionalista vasco se deje arrastrar por esa estrategia

para qué estamos en una ponencia de autogobierno es que estas cosas que supuestamente entendemos

en una hipotética reforma del estatuto de autonomía por su dimensión por su importancia resulta que se nos hurta la posibilidad de debatir sobre ella
en el seno de la ponencia de autogobierno me parece sorprendente eskerrik asko y termino señora presidenta besteen

en su estrategia y la segunda qué hacemos en la ponencia de autogobierno muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

pues yo también le he escuchado atentamente en la primera intervención y en la réplica pero hay algo que no me cuadra

esta es la agenda social que bildu proclamó en su boca no hace muchos días que quería instalar

en esto se concreta aquella reflexión que ustedes hicieron aterrorizados por el revés electoral de las elecciones generales con podemos en esto se va a concretar la nueva política que ustedes quieren poner encima de la mesa en euskadi en seguir empantanados en la vieja política de siempre

pues en fin yo creo que no se corresponde mucho lo que usted anunció solemnemente en aquel discurso

aquí y que no responde para nada por mucho que usted lo quiera adornar

de relaciones personales no sabe usted que eso es una farsa y un teatrillo que han montado ustedes y poquito más

de que aprobar esta fantasmal consulta significa que inmediatamente se solucionan todos los problemas que en el mundo han sido y la sociedad vasca se convierte en una especie de arcadia feliz por mor del derecho a decidir porque en ese sentido ustedes que han tenido oportunidad de gobernar en gipuzkoa como aquí se lo ha recordado en fin tendríamos en este momento la arcadia feliz

y parece que no ha sido precisamente ese el resultado de su gestión política esto al final señor arraiz es distraer es engañar esto es la demostración

sinceramente espero que esto fuera así no son capaces de cambiar

no son capaces de conectar con las verdaderas necesidades de los ciudadanos vascos

que esconden por desgracia la incapacidad más manifiesta para cambiar su forma de hacer política porque esto no es el bálsamo de fierabrás

desde arriba hasta abajo todos y cada uno de los problemas que afectan a los ciudadanos vascos no lo es crea otros nuevos como ustedes saben perfectamente y después esa especie de afirmación angelical de que a los ciudadanos se les puede preguntar sobre todo sobre cualquier cosa sin límite alguno

por poner un ejemplo bastante peregrino porque no deja de ser una pregunta cualquiera sobre algo

por cierto mal diseñado y peor ejecutado pero nada más eskerrik asko pastor jauna eztabaida

legebiltzarkideok lehendakari jauna señorías empezaremos por declarar el apoyo del grupo parlamentario socialista al colectivo de enfermería y asegurar nuestro compromiso para resolver los graves problemas que en este momento ha creado y añadido a los que pudieran tener como colectivo

de prescripción enfermera porque hasta entonces el colectivo de enfermería problemas evidentemente por sus aspiraciones a colaborar más en los servicios sanitarios de salud a los que querían aportar tanto sanitariamente

y que tenían como décimos problemas para avanzar en estos caminos pero sobre eso

el decreto ley novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince que ha venido como digo a agravar un problema que en su inicio pretendía resolver

prescribiendo medicamentos para determinados problemas mediante protocolos y guías clínicas aprobadas pero no tenían refrendo legal

se suponía que les iba a dar un refrendo legal y jurídico el decreto que por cierto se trabajó con todas las personas interesadas

de las comunidades autónomas los sindicatos colegios generales de enfermería de médicos y tenía el apoyo como digo y la colaboración de todos pero en el último momento y con alevosía es decir

de los que hasta entonces habían trabajado en el borrador se modifica le quita todas las competencias a la prescripción enfermera aquellas como décimos que venía aplicando desde hacía muchos años y que se suponía que este decreto ley

iba a garantizar jurídicamente eran muy importantes significaban restar poder al médico pues yo creo que no que el desarrollo de esas competencias que venía ejerciendo la profesión de enfermera realmente colaboraban con el médico de nuevo y hay suficiente trabajo como para poder repartir una parte pequeña al colectivo de enfermeras qué hacía el colectivo de enfermería en materia de prescripción pues proponían medicamentos sin receta médica proponían los medicamentos que había que incorporar en las curas

proponían medicaciones en aquellos casos en los que había un protocolo y unas guías clínicas

proponían la revisión y el control medicamentoso de los pacientes crónicos por tanto

de aportaciones que hacía el colectivo de enfermería realmente suponía una gran aportación a los sistemas nacionales de salud y a los pacientes que se han visto

los colectivos de enfermera porque ahora con el real decreto esos protocolos no son válidos

tampoco y la enfermera solo podrá administrar lo prescrito por el médico y escrito en la historia clínica y quien prescriba medicación al margen del decreto ley cometerá un delito qué ha ocurrido en euskadi pues

había enviado un mensaje a las enfermeras anunciándoles que había un periodo transitorio que tranquilas

transitorio para no asumirlo y que no pasaba nada porque había una póliza de responsabilidad civil

así exactamente porque una póliza de responsabilidad civil no puede cubrir un delito penal que es personal e intransferible no hay responsabilidad civil

un delito un delito y eso no lo digo yo solo es que

a los recursos presentados por el colegio general de enfermería les dice taxativamente al colegio en sus alegaciones le dice ustedes los enfermeros venían cometiendo un delito venían

prescribir medicamentos sin amparo legal porque el amparo legal solo lo tienen los médicos

por tanto a partir del real decreto no hay periodo transitorio que valga no hay hagan ustedes como que no existe el real decreto sigan trabajando que osakidetza les garantiza a ustedes una póliza de responsabilidad civil

pero el decreto el decreto ley hay que cumplirlo y digo que hasta el veintisiete porque bruscamente el veintisiete de enero el consejero

con representantes de la mesa de diferentes representantes de enfermería

el recurso lo cual nos parece muy interesante hacer este recurso pero hasta el veintisiete de enero estaban ustedes en que no hacía falta

por qué se iba a debatir en el parlamento por qué venían las presidentas de los tres colegios de enfermería a la comisión de salud

no hay recurso presentado cómo se llamaba esto postureo no sé exactamente ayer

las tres presidentas de los tres colegios profesionales de los territorios históricos nos relataron a su juicio y con las asesorías jurídicas que poseen la situación de la enfermería que voy a resumir en dos falta de capacidad legal para prescribir cosa que ya sabíamos y le piden a osakidetza respeto

para las que no tienen capacidad legal porque suponen como décimos la comisión de un delito y que no hay póliza de responsabilidad civil que pueda compensar

el abogado del estado que sus palabras fueron exactamente eso en la alegación acusa a los profesionales de enfermería de haber cometido presuntamente ilícitos penales

quién salva esto claro los perjudicados son los pacientes del servicio nacional de salud y naturalmente los gestores

servicios nacionales de salud que han perdido de golpe la gran aportación del colectivo de enfermería dirigida directamente a los pacientes a los tratamientos y a las vacunas porque aquí el abogado del estado dice que las vacunas se pueden saltar que las pueden poner las enfermeras si quieren pero las vacunas por ejemplo

a personal en principio de riesgo requieren una valoración previa

y decidir si ese paciente que ya tiene un diagnóstico de insuficiencia respiratoria y que viene tosiendo está en condiciones de recibir la vacuna de la gripe luego tampoco

sugiriendo que existe una autoridad sanitaria que lo ha declarado previamente

en el primer borrador del real decreto una falta de respeto también hacia el colectivo de enfermería hacia su preparación profesional hacia la gran aportación que venían haciendo a los pacientes en todo el territorio nacional y en todas las diferentes comunidades autónomas por ello

en la comisión de salud y en este parlamento nos hemos puesto de acuerdo para firmar una enmienda que resumo a ustedes en varios puntos primer punto el parlamento vasco rechaza el decreto ley novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince

porque aunque el recurso es una medida

la derogación del decreto segundo punto el parlamento vasco hace un llamamiento al gobierno vasco

acelere el anunciado recurso contra este decreto y que trabaje en la defensa de nuestras competencias y de la defensa de las funciones de la enfermería tercero el parlamento se compromete mediante la comisión de salud y consumo a ponerse en contacto

del resto del estado para hacer llegar entre todos una petición conjunta de derogación es decir no le ponemos solo deberes al gobierno nos ponemos también deberes todos los parlamentarios el parlamento insta al consejo de salud a comunicar perdón al consejero de salud a comunicar a los colegios médicos

al igual que lo ha hecho con el colectivo de enfermería a explicarles la posición del consejero

al decreto ley novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince quinto el parlamento insta al gobierno para que utilice todos los medios legales y normativos

y su práctica profesional se desarrolle con todas las garantías sin que se vean obligadas a realizar conductas que les pongan en riesgo tanto a nivel personal como profesional

en este periodo de sesiones un plan que recoja todas las funciones que la enfermería va a desarrollar en euskadi dicho plan debe explicitar el rol

tanto en hospitales como en centros ambulatorios que realizan consulta especializada porque ya vimos en la interpelación que

las enfermeras habían avanzado mucho en la competencia enfermera desarrollaban consultas autónomas y esa era una tarea que se tenía que generalizar y desarrollar en el ámbito de la atención especializada

que en el plan se recoja las tareas los objetivos y losplanes que van a hacer para que la enfermería pueda desarrollar su tarea en la atención especializada

que debe especificar la participación enfermera y su rol

en la organización estructural y gestión de las osi incorporando este colectivo a los órganos de decisión

fueron realizadas la mayoría de ellas ayer por las tres representantes de los colegios de enfermería de los tres territorios a ella nos sumamos los miembros que hemos firmado esta enmienda a los cuales agradecemos su aportación y mejora

de las propuestas iniciales así como que solicitamos al resto que no han participado en la confección de la enmienda o no la han firmado por los motivos que considere oportunos si quieren

eta prozesu asistentzialetan pues decía que por una parte agradecer que en el texto

que tuvimos ocasión de escuchar en la interpelación porque más bien en la interpelación oímos un rifirrafe entre la

el cese de la directora de enfermería y la situación concreta en este

en el que se especifiquen y se concreten las funciones y el papel de la enfermería si que no ha sido así a lo largo de la defensa del debate de la iniciativa concreta y por eso también nosotros en nuestra enmienda la enmienda que presentamos nos centramos en el plan de enfermería como

de acuerdo estamos de acuerdo con la elaboración y que el gobierno vasco elabore de un plan de enfermería donde se especifiquen se concreten el papel de la enfermería

la enfermería la evolución del papel de la enfermería en la sanidad

al colectivo de enfermería como creo que este grupo también lo ha hecho siempre en este parlamento a través también de numerosas iniciativas y también en contacto permanente con el colectivo en concreto y con los sindicatos que representan a estos

sanitario a lo largo de todo el proceso asistencial y en los ámbitos concretos de atención primaria

la rehabilitación en la atención especializada en las urgencias en la atención domiciliaria que cada vez vemos que además esa atención cobra más importancia debido al número de personas dependientes

precisan a una atención en el propio domicilio la importancia de la enfermera también en la continuidad de cuidados y en la coordinación de los distintos niveles asistenciales pero dicho esto también tengo que decir que el pasado

octubre de dos mil quince se dio luz verde al real decreto al que se ha hecho referencia en la intervención

era una competencia prevista en la legislación del dos mil nueve contemplada actualmente en el texto refundido

y productos sanitarios del real decreto uno barra dos mil quince de veinticuatro de julio con este real decreto la capacidad de prescribir medicamentos sujetos a prescripción médica sigue siendo de los médicos odontólogos y podólogos

novedad ninguna pero sí que hay que decir que la novedad está en que se han atribuido competencias a los enfermeros con dos tipos de actuaciones concretas en donde había un vacío normativo una laguna

por tanto una falta de regulación muy concreta por lo tanto se ha legislado y este real decreto lo que ha hecho es legislar allá donde había

vacío legal facultando para de forma autónoma indicar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios

y la facultad de indicar usar y autorizar determinados medicamentos sujetos a prescripción médica una vez que se regule la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial

y validados por la agencia de calidad del sistema nacional de salud esta facultad será objeto de seguimiento por parte del profesional sanitario que haya determinado

clínica de indicación a los efectos de su adecuación al mismo así como de la seguridad del proceso y de la efectividad del tratamiento por lo tanto quiero recalcar que este real decreto obedece

histórica de los profesionales y que forma parte de los acuerdos por la sostenibilidad y calidad del sistema nacional de salud suscritos por el ministerio de sanidad el consejo general de enfermería

regula tanto la elaboración de protocolos y guías de práctica clínica como la acreditación de los profesionales

concretos del real decreto porque tengo entiendo que todos ustedes también han tenido ocasión de leerlo pero sí que hay que decir que estos profesionales gozarán ahora previa acreditación de la competencia

y de productos sanitarios que hasta ahora no estaba reconocido

sujetos a prescripción médica se establece teniendo en cuenta la seguridad del proceso

que me parece muy importante porque creo que es lo que hay que tener en cuenta al regular este tipo de cuestión esto está protocolarizado y requiere de las instrucciones de tratamiento que debe figurar en la historia clínica según

paciente por lo tanto creemos que con este real decreto ley se ha intentado mejorar la situación legal y de seguridad del personal de enfermería creemos que es algo que sin duda contribuye a mejorar la seguridad jurídica no solo de los profesionales sino también del paciente y de toda la cadena del proceso asistencial como he hecho referencia a lo largo de mi intervención se regulaban aspectos que no estaban regulados regulación de la indicación

como decía que era una demanda histórica era necesario y creo que además ha sido muy gráfica la referencia de la señora roncal al informe de la abogacía del estado era necesario un desarrollo normativo

colectivo y creo que no se ajusta a la verdad señalar que con este real decreto se deja de desarrollar o que se coartan las funciones de enfermería atendiéndonos a una cuestión de legalidad y de seguridad jurídica sí me parece importante y antes de finalizar hacer una precisión

es un profesional el que con competencia de prescripción de acuerdo con al artículo setenta y nueve punto uno del real decreto uno barra dos mil quince

normalmente un médico el que prescribe una

pero creo que hay que diferenciar este supuesto de lo que es una campaña de vacunación como es la gripe en la que hay un riesgo epidemiológico y se da una instrucción

y por lo tanto cuando se vacuna a la población en el marco de una campaña de vacunación como es la de la gripe se actúa fruto y como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria porque se ha detectado un riesgo epidemiológico

lo que no requiere un diagnóstico previo porque no hay enfermos y puesto que ya están identificados los cohortes más expuestos a ese riesgo en el caso de la gripe se identifican a los mayores de sesenta y cinco años profesiones sanitarias y en contacto con la población que son los que deben ser inmunizados por orden de la autoridad sanitaria que en este caso suple a esa orden o prescripción facultativa también

en mi segunda intervención una referencia a todas las actuaciones que se han realizado por parte del ministerio en relación a la protección de este colectivo

su papel en el sistema nacional de salud pero para finalizar sí quiero decir que hemos tenido conocimiento de una enmienda de transacción nosotros estamos de acuerdo y vamos a pedir

separada por puntos y pediríamos la votación separada del último punto puesto que era el objeto de la iniciativa la elaboración por parte del departamento de un plan que recogiera las funciones de enfermería es lo que hemos recogido en nuestra enmienda de transacción estamos de acuerdo con ese punto
vuelvo a recalcar creemos que era el objeto de la iniciativa y por lo tanto votaremos a favor de dicho punto besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak

por lo tanto nuestro grupo está a favor de que se deba profundizar en la autonomía de las y los profesionales de enfermería y también mejorar sus capacidades y funciones

siempre nos hemos mostrado a favor de que se recogiera en un texto legal la prescripción de enfermería en consecuencia

porque no compartimos su contenido y mucho menos aún el procedimiento seguido por el ministro alonso para su aprobación de hecho

adquirido por su predecesora para regular la prescripción de la enfermería en esta legislatura

pero haciendo trampas y aprobando en el último momento un texto que no era lo acordado en el consejo interterritorial de sanidad con el visto bueno

porque no puede ser que en el último paso de la tramitación del decreto se modifique unilateralmente el texto introduciendo párrafos y contenidos que no contaban con el visto bueno ni de las comunidades autónomas ni de las y los representantes de la enfermaría provocando como es lógico su indignación al sentirse minusvalorados y traicionados

de calidad y con seguridad para las personas usuarias de nuestro servicio de salud pero también garantizando la seguridad de todas y todos los profesionales de osakidetza arrazoi horiengatik guztiengatik uste dugu

únicamente para decir que compartimos lo fundamental de lo que se refleja en esa enmienda de transacción y por lo tanto

sí si me lo permite desde el escaño señoría únicamente para ratificar nuestra alegría y que compartimos con el resto de los grupos que han firmado esta transacción nos parece

incluso agradecemos y consideramos que es importante que el grupo que apoya al gobierno también esté en este proyecto común y consensuado porque

instado al departamento de salud que cumpla suponemos que los asumirá de inmediato y el resto de tareas que nos hemos puesto nosotros mismos

inmediatamente nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

motivadas más por otros intereses partidistas y por echar balones fuera

también con elpartido popular que no ha firmado la enmienda de transacción que es que el gobierno vasco elabore

las funciones y el papel de la enfermería he recalcado la importancia del papel de la enfermería en todo el proceso asistencial pero me quedaba pendiente en la primera intervención porque creo que es de justicia reconocer

relacionados con la enfermería creo que han sido muchos incluso este último

que trata de resolver un vacío una laguna

la referencia de la señora roncal al informe de la abogacía del estado soporte de las alegaciones en donde se dice claramente

real decreto lo que aporta es mayor seguridad jurídica no solo a los profesionales

de enfermería sino al paciente y a toda la cadena asistencial me voy a referir a los acuerdos muy brevemente acuerdo del ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad con el consejo general de enfermería y el sindicato satse al que he hecho referencia en mi intervención

pacto por la sanidad recursos humanos y gestión clínica creación del registro estatal de profesionales sanitarios mediante el real decreto

regulación de los diplomas de acreditación y acreditación avanzada mediante otro real decreto establecimiento de los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación

constitución del foro profesional junto con los médicos en marzo de dos mil quince con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad asistencial y las condiciones del ejercicio de estas profesiones elaboración y publicación de la guía de bioseguridad para los profesionales sanitarios

como digo para establecer una regulación allá donde no la había y dar

de la que carecía este colectivo en el desarrollo de sus funciones es una petición espero que sea aceptada la de poder el último punto que creo que era el objeto de este debate que era la elaboración de ese plan

a día de hoy todavía pendiente por parte de este gobierno eskerrik asko garrido

gracias señora presidenta buenos días a todos

empezar esta intervención diciendo que en esta tierra sabemos bien lo que el terrorismo provoca hoy mismo en este parlamento

víctima del fanatismo terrorista y es que este parlamento ha sido testigo de los efectos que provoca el terrorismo en una sociedad democrática y ha sufrido

de quienes se empeñan en utilizar la violencia y en llevarse por delante las vidas humanas sin inmutarse el

y numerosas familias rotas destrozadas de por vida por culpa de la locura de una fanáticos que durante años quisieron someter a esta sociedad

en euskadi nos ha tocado enfrentarnos a este tipo de situaciones durante muchos años

ha sido testigo también del enorme desgarro que el terrorismo ha provocado en la sociedad vasca

demos lo importante que es la respuesta que los demócratas demos tenemos la tarea como sociedad de ser capaces

de hacer un relato que haga justicia con quienes sufrieron el daño terrorista y que señale a los culpables que son

los únicos culpables son los terroristas porque esa es la única manera de evitar que el terrorismo florezca reconociendo a las víctimas y señalando a los culpables y la manera de vencer al terrorismo es vencerlos con determinación

no cediendo ante los violentos plantándoles cara en la calle y la sociedad vasca ha sido capaz de vencer al terrorismo y de hacerlo con tesón con valentía con dignidad

por encima de cualquier otra cosa cuando ese paso firme y constante de la sociedad vasca ha sido acompañado del respaldo institucional de la unidad de todos los partidos democráticos

mucho más grande el paso ha sido enorme y decisivo una unidad que quedo clara en el pacto de ajuria enea pacto en el que expresamente se ponía de manifiesto

contra el terrorismo posteriormente se firmó el pacto por las libertades y contra el terrorismo

que no quisieron estar en ese pacto como por ejemplo el partido nacionalista vasco y esa unidad de acción

yihadista porque el terrorismo no entiende ni de fronteras ni de tiempos el terrorismo es igual

aparece donde y cuando los fanáticos deciden abrirse paso de la única manera que saben con bombas y con tiros

porque ese es el único y su principal objetivo hacer daño sembrar violencia y sembrar miedo europa se ha convertido en uno de los principales objetivos

vidas humanas una expresión cruenta de ese fanatismo fue el atentado en pleno centro de parís el pasado trece de noviembre que se cobró ciento treinta muertos y más de trescientos cincuenta heridos como dijimos en la interpelación que ha dado base a esta moción

ese viernes toda europa toda españa y toda euskadi quedábamos impactadas los ataques terroristas iban sucediendo y el número de víctimas mortales iba creciendo minuto a minuto

con más atentados como decía europa españa y euskadi están también en el punto de mira de los terroristas la respuesta que a ese atentado de parís tuvo la sociedad francesa como en otras partes de europa y del mundo fue ejemplar

a dejar claro su rechazo al terrorismo y a demostrar que no está dispuesta a dar

como digo también tuvo respuesta en otras ciudades importantes y la tuvo también en euskadi pero esa respuesta necesita ser acompañada de una posición clara y contundente de las instituciones democráticas de una respuesta unánime y clara de los partidos democráticos y con ese propósito es con el que se firmó el pacto de estado contra el terrorismo yihadista que fue firmado por el presidente del gobierno y el líder del partido socialista semanas después de los atentados

se hizo por la obligación política de reforzar la posición de rechazo al terrorismo expresada en la calle de tomar conjuntamente medidas de todo tipo judiciales policiales y legales contra el terrorismo un acuerdo como digo al que con posterioridad han sido firmando otras fuerzas políticas que han creído

contra los terroristas el repudio social que provoca los terroristas

tiene que estar acompañado de la unidad de los partidos políticos que defendemos la convivencia

tiene que estar acompañado sin poner excusas para no realizar ese acompañamiento

consideramos que eso es un paso fundamental porque como decía al principio de mi intervención en euskadi sabemos muy bien cuánto

todos juntos y ese ejemplo nos tiene que servir de estímulo para defender que sí que es importante la unidad política que es importante la unidad de acción

sino también en las medidas para actuar contra este tipo de terrorismo no podemos entender porque no es razonable que esta cámara tardará

en condenar los atentados de parís y que cuando lo hizo

otras cuestiones para expresar esta condena ni intereses políticos partidistas ni intereses de otro tipo cuando hablamos de hacer frente a la violencia y el terrorismo porque no se puede pretender

no se puede pretender evitar contextualizar el terrorismo en euskadi

que quien parece padecer una amnesia interesada pretenda convertirla en una amnesia colectiva es verdad que hay en esta cámara quien todavía quiere sin querer reconocer el pasado terrorista de esta tierra quiere seguir sin condenar ese pasado y para ello no condena otros presentes

porque ese pasado no desaparece porque algunos no quieran mencionarlo

sufrido ese pasado está ahí y ese pasado es necesario reconocerlo y contarlo como fue sin tergiversarlo y en ese pasado pudimos ver

que lo importante es acompañar el paso democrático y de defensa de las libertades

el pacto por las libertades y contra el terrorismo no entendemos que en situaciones como estas haya quien prefiera quedarse de lado porque estas situaciones exigen compromiso el mismo que durante años hemos demostrado la sociedad vasca actuar conjuntamente y eso es lo que representa el pacto antiyihadista actuar conjuntamente situaciones como esta exigen que esta cámara exprese claramente que como representantes de una sociedad que durante demasiados años ha sufrido el fanatismo terrorista siente de forma especial las agresiones

condena rotundamente toda forma de violencia e intolerancia y muestra su compromiso con los valores cívicos que sitúan a la vida y la libertad de las personas por encima de cualquier credo o causa era el primer punto de nuestra moción al que ha sido modificado en una enmienda transaccional firmada con el grupo upyd y con el grupo socialista a quienes desde ahora

en segundo lugar creemos que debemos realizar un pronunciamiento sobre la consideración de europa como un espacio de diálogo respeto y cooperación entre diferentes huyendo de todo totalitarismo y fanatismo y por último emplazábamos en nuestra moción al lehendakari a que impulse entre las fuerzas no firmantes la incorporación al pacto contra el terrorismo yihadista este punto también ha sido modificado en esa enmienda de transacción en el que se insta al gobierno de españa a que consiga puntos de encuentro y también al lehendakari a que esos mismos puntos de encuentro se den en euskadi

con el objetivo de la unión de todos y de todas las acciones a realizar contra el terrorismo yihadista es momento de decir claramente si se quiere participar de forma proactiva en la lucha contra la intolerancia yihadista o si no se quiere hacer un frente común contra ese terrorismo es así de claro y así de contundente si se quiere estar de frente

porque no entendemos que haya quien prefiera ponerse de perfil que no quiera dejar su firma en un acuerdo que lo que busca es responder de manera unitaria y firme al terrorismo y menos como digo cuando en euskadi hemos soportado durante tantos años

nadie nadie entendería que el paso de las instituciones de las que depende este acuerdo político sea más corto que el de los ciudadanos porque frente al terrorismo como se llame como decía lleve capucha o turbante venga de aquí o de allí se le combate con unidad política e institucional

ese es el objetivo que perseguían del acuerdo yihadista y algunos tendrán que explicar qué es lo que no comparten de esa finalidad que persigue ese acuerdo del pacto contra el terrorismo

por ello nos parecía importante que el lehendakari impulsara la incorporación de las fuerzas políticas no firmantes en ese acuerdo como instrumento de unión de todos los demócratas

reusó hacerlo y ahora se lo volvemos a pedir confiamos en que la moción salga adelante y confiamos en que quien ostenta la responsabilidad de gobierno de las principales
instituciones vasca sepa estar a la altura nada más muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta me parece interesante una de las últimas cosas que ha planteado la señora llanos

que explique en sede parlamentaria las razones por las cuales no se suma al pacto antiyihadista para que el resto de grupos podamos explicar cuáles son las nuestras

el partido nacionalista vasco para firmar ese pacto antiyihadista porque efectivamente algún grupo puede plantear que ese pacto tiene determinadas carencias

y cualquier partido político puede explicar las razones por las cuales considera que ese pacto antiyihadista no vale para los objetivos que trata de alcanzar pero yo lo que pido al señor egibar o a quien intervenga del grupo nacionalistas vascos que explique perfectamente bien las razones por las cuales no se suma al pacto

yo estoy fundamentalmente de acuerdo con la moción planteada por el grupo popular aunque pensaba que era mejorable y hemos tratado de hacerlo a través de nuestra enmienda de totalidad qué era lo que nosotros queríamos expresar sobre todo y a diferencia

en esa enmienda de totalidad la necesidad de que el pacto antiyihadista no sea una mera foto propagandística

que esta reflexión o esta idea se incorpore a esta enmienda de transacción más allá de que estemos de acuerdo con ella pero creo que

la idea de que el pacto antiyihadista no sea una simple foto propagandística que no se quede ahí más allá de que la unidad política genérica importante pensamos que ese pacto tiene que tener un contenido claro y unos objetivos a alcanzar y así lo hemos expresado en nuestra enmienda y en concreto en el último punto de ella cuando decíamos que ese pacto

asegurar los recursos materiales humanos y presupuestarios realmente necesarios y el desarrollo de una ambiciosa y global estrategia antiterrorista que no limite el combate contra sangre y amenazas a meras fotos propagandísticas evidentemente en esa enmienda cuáles son todas las medidas que debería incluir ese pacto pero creo que las hemos dejado apuntadas en esa enmienda es por cierto lo que upyd ha venido diciendo

dos mil quince cuando en principio fue crítico respecto a ese pacto y cuando finalmente

nos parece importante no solamente decir que se está en contra del terrorismo yihadista sino sobre todo en fin incrementar los recursos materiales humanos

algunas ideas claras que quiero expresar en esta tribuna debemos hacer

contundente y lo más amplia posible al menos de las fuerzas democráticas de este parlamento del terrorismo yihadista y de sus crueles métodos debemos mostrar cercanía respecto de las víctimas o posibles víctimas

o masacradas por los terroristas sean estos ancianos mujeres o niños jóvenes o mayores

personas libres o personas que simplemente pasaban por allí cuando decidieron poner una bomba o apretar

debemos llevar a cabo una defensa inquebrantable sin complejos del sistema democrático que disfrutamos

tanto nos costó conseguir de los derechos humanos del pluralismo político de la convivencia ciudadana entre personas que podemos pensar distinto hablar una lengua diferente o procesar religiones distintas pero que merecemos todas el mismo respeto puesto que todos somos personas debemos llevar a cabo una defensa sin fisuras ni dudas de la libertad de expresión

y que sin embargo debe ser por todos respetada de la libertad

nuestra propia vida y más en concreto y en relación al pacto antiyihadista ya firmado por los principales partidos políticos españoles

nosotros queremos como decía al principio que no sea una simple foto propagandística que no se quede ahí más allá de que la unidad política y reflejarla sea también importante

en palabras debe tener un contenido debe asegurar medios materiales humanos y presupuestarios suficientes debe facilitar a nuestras policías a todas ellas los medios adecuados para poder realizar su labor correctamente

debe articular una estrategia global de la mano del resto de los países europeos porque este no es un problema local y de los países democráticos de nuestro entorno debe ir a las causas también debe ir a las causas debe fomentar y trabajar la prevención debe perfeccionar

debe asegurar que se aplique la ley con todas las garantías debe incluir también actuar en origen para solucionar los problemas que existen en esos países de donde viene el terrorismo yihadista debe incluir una intensa pedagogía sobre las diversas facetas de los riesgos y amenazas radical comporta y debe trabajar evidentemente la educación los valores humanos y los principios democráticos debe actuar por lo tanto en el corto plazo pero también en el medio plazo

para prevenir el terrorismo yihadista para impedir que el terrorismo avance

este desafío requiere valor liderazgo y una verdadera voluntad política para desarrollar una estrategia antiterrorista

a meras fotos propagandísticas expresión que hemos querido incluir en nuestra enmienda este desafío por lo tanto requiere unidad posible voluntad política y altura de miras para defender la democracia e impedir a su vez que la democracia que disfrutamos no se vea

es entendible que el grupo eh bildu no se sume a ninguna iniciativa que trate

a cualquier tipo de terrorismo teniendo en cuenta cuál es su pasado reciente en relación al terrorismo de eta en todo caso creo que es importante que el partido nacionalista vasco

con su voto como partido político democrático que es creo que es importante que el partido nacionalista vasco se sume a esta iniciativa a pesar de que no haya presentado

y si el partido nacionalista vasco tiene disposición a votar en contra de esta iniciativa o se opone al pacto antiyihadista lo que pido al portavoz que intervenga

perfectamente bien las razones por las cuales no está de acuerdo con este pacto antiyihadista que no utilice

la prisión permanente revisable algo que no habilita este pacto sino el código penal que no utilice

cuáles son las razones por las cuales no se suma al pacto o no vota a favor de esta iniciativa nosotros nos sumamos a esta iniciativa y nos sumamos al pacto antiyihadista como elemento que puede ser útil para hacer frente a los terroristas inmenso desafío que a todos nos afecta gracias

es muy libre de traer para su debate los asuntos que considere más oportunos pero sinceramente hay algunos cuya utilidad

sobre todo si pensamos en lo que puede o no puede hacer este parlamento y en lo que nos demanda la ciudadanía vasca es más que conocida la postura de los socialistas vascos y del socialismo en general

sus bárbaros atentados nos recuerdan un día sí y otro también

y estamos en el acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en contra del terrorismo más conocido como pacto antiyihadista que se firmó en febrero del pasado año

a pesar de no estar de acuerdo con la concreción que introdujo el partido popular en uno de sus puntos porque siempre hemos estado en contra de quienes pretenden dinamitar nuestra convivencia y hemos buscado la forma más adecuada para hacerles frente desde el respeto a la ley

lo hemos hecho con quienes utilizan el islam como coartada para la barbarie y lo haremos con cualquier otra amenaza similar ahora bien señora llanos tengo que decirle que mi grupo no entiende muy bien lo que pretende al traer a estas alturas la moción que ha presentado quiero recordar

y la apelación a que se sumen al pacto los partidos que no han querido hacerlo viene de una interpelación que ha recordado usted al gobierno vasco sobre sus intenciones de participar

las cuestiones están relacionadas por supuesto pero no le vemos una consecuencia lógica y aunque valoro créame que se lo digo sinceramente su elocuencia y su tesón

suscriban hoy sin motivo concreto alguno una declaración que rehusaron con motivo de los graves atentados contra la revista charlie hebdo o los de parís

aludidos del mismo modo tampoco considero que quienes han evitado todas las ocasiones que han tenido en un año de sumarse al pacto antiyihadista lo vayan a hacer ahora aunque recurra usted a los buenos oficios del lehendakari sinceramente

muy receptivo ante esta encomienda habrá que concluir por tanto que el grupo popular ha querido hacer como otras veces testimonialismo buscando atraer los focos

y no nos parece ahora la estrategia más propicia para forjar aproximaciones y consensos y hasta dudo perdone que le diga de su buena fe y la de su partido sobre todo después de ver al ministro de exteriores en funciones señor garcía margallo

ayer mismo el pacto antiyihadista para tratar de desprestigiar internacionalmente el intento de pedro sánchez de formar gobierno de hacer eso que el señor rajoy ni siquiera se ha tomado la molestia de intentar eso es responsabilidad sí señora

eso es sentido de estado eso es dejar fuera de la lucha política los grandes consensos algo que se proclama en la teoría y que después se incumple en la práctica

que su partido hace esto porque no dudaron en utilizar la lucha contra el terrorismo y las víctimas para debilitar al adversario político en este caso otra vez también

sí reiteraré que los socialistas seguiremos estando en todos los acuerdos para defender la convivencia democrática de forma limpia

responsable sin tentaciones electorales como las que ustedes padecen cada cierto tiempo primero por convicción y después porque consideramos que en momentos de conmoción de amenaza la ciudadanía necesita confianza y seguridad y una forma de ofrecerla es ver a sus representantes aparecer

pero estar juntos contra el fanatismo de cualquier tipo no significa ni mucho menos compartir todas y cada una de las medidasconcretas que en un momento dado plantea

y quien tiene capacidad de establecerlas eso lo entiende cualquiera que quiera entenderlo los socialistas estamos por una respuesta unida al yihadismo por supuesto

sea revisable o no las dos posiciones no son incompatibles de hecho poco después el grupo socialista en el congreso presentó un recursode inconstitucionalidad contra la ley de la prisión permanente revisable el pacto establece en su punto dos

se les aplicará la máxima pena privativa de libertad recogida en el código penal

por el pp es la prisión permanente revisable por el partido socialista ya se hizo constar en ese mismo acuerdo

así como su compromiso de derogar en cuanto pudiera dicha pena lo que no entendemos por tanto es los problemas de algunos otros partidos para conciliar ambas posiciones algo que resulta muy fácil de explicar si se está de acuerdo en penalizar la captación y el adiestramiento de terroristas como parece que sí

dotándolos de medios en proteger a las víctimas en luchar y prevenir contra cualquier forma de radicalización violenta o en mejorar internacional en esta materia si se está de acuerdo en todo esto que es el pacto antiyihadista no se comprende la negativa de algunos a firmarlo por un aspecto

una salva guarda entendemos la salvaguarda la

o el inconveniente o la oposición frontal en el caso de bildu por las cuentas pendientes que arrastra con su pasado pero es muy difícil de comprender en el caso del partido nacionalista vasco

de la firma de este acuerdo se reclama airadamente el derecho a estar en todos los foros y en todos los órganos de coordinación que se creen precisamente en aplicación

en esa foto de unidad por razones que podemos sospechar para mantener su pureza nacionalista

claramente no quiero mojarme ni comprometerme en una foto de la que me pueden acusar de ser poco nacionalista

alegando que no se les ha invitado porque no es cierto los socialistas vascos somos coherentes con nuestra trayectoria y con nuestros compromisos por eso aunque ya hemos dicho que este debate nos parece extemporáneo y estéril además

según los términos recogidos en la enmienda que afortunadamente hemos conseguido firmar con el grupo popular y con upyd

para aquellas personas que no hayan leído el texto del acuerdo les diré que es un texto que se puede esperar de dos partidos cuya idea de libertad

la idea orwelliana en la que se desarrolla el texto del pacto es sencilla

y se le intenta convencer al pueblo de que a mayor seguridad

conceptos utilizados casualmente por aquellos que limitan los derechos políticos sociales laborales y democráticos de su propio pueblo

dijo la siguiente frase esta ley no será utilizada solo contra el yihadismo es un arma de destrucción masiva de derechos especialmente en manos de un ministro de extrema derecha

no hará a españa más segura sino al contrario tendremos una democracia mas tutelada y más amordazada incluso un compañero del señor maneiro en madrid decía que pp y psoe solo buscan mantenerse en el centro de la información política para que solo se hable de ellos posteriormente

encontró acomodo como usted mismo en dicho texto parece que usted también quiere que se hable de usted egia esan testua nahiko interesgarria da

akordio errepresibo bat eta sorgin ehiza dute helburu como creo que para discutir sobre un tema en política hay que tener toda la información considero que hay que poner encima de la mesa un análisis más sesudo de aquello

es un término nuevo inventado por occidente para referirse tanto al islamismo radical o salafismo término más apropiado

contra intereses extranjeros o contra la población de dichos países extranjeros una vez que lo hemos identificado debemos pasar a conocer qué es lo que ha provocado el ascenso del salafismo no solo en el próximo oriente sino también en europa asia y áfrica no será difícil de recordar para ustedes cómo durante los años sesenta surgen en todo el mundo árabe un movimiento laico nacionalista de corte marxista

de la exigencia de mayores libertades y progreso social expulsando a los gobernantes que los países colonizadores europeos habían colocado en el poder seguramente que algunos de ustedes durante los años setenta apoyaron dichos movimientos aunque ya

eta korearekin batera pero entre medias quedó un territorio a controlar roosevelt y las petroleras americanas entendieron que sería claves en las décadas siguientes y así lo ha sido

inglaterra peleó con estados unidos y perdió y solo pudo mantener el control sobre aquello que ya venía monitorizando a través de su política colonizadora ejemplo

siria y se configuraba el estado de israel como antes les he dicho en los años sesenta nacía el panarabismo movimiento que no vieron con buenos ojos los ministros de exteriores americanos y que al igual que ocurriría décadas después en otros lugares del globo el departamento de estado yanqui

y amenazas comerciales también es cierto que en muchos países el panarabismo y sus gobiernos y sus gobernantes fueron ejemplos de corrupción

a los movimientos islamistas enemigos de la laicidad y del progreso comienzan los gobiernos sátrapas aliados de estados unidos y de israel pero no perdamos de vista que durante

de la región seguía haciendo millónes de dólares con la venta de petróleo ese país es arabia saudí recordemos que es la propia arabia saudí en donde surge la visión guajadista dentro del salafismo

los años pasan entre guerras golpes de estado intervenciones militares ilegales de la otan millónes de personas desplazadas ocupaciones ilegales de países y de tierras implantación de bases militares de los estados unidos expolios de pueblos enteros por parte

y al qaeda y llegamos hasta nuestros días los datos oficiales nos dicen varias cosas datos que son realizados por observatorios internacionales y por personas autorizadas en la materia como patrick cogburn karen armstrong

incluso por los servicios de inteligencia occidentales decía que esos datos nos dan una visión no solo completa sino fundamental a la hora de abordar el yihadismo internacional

de la venta de hidrocarburos han sido utilizados para financiar la implantación del guajadismo desde afganistán

entre otros muchos arabia saudí hoy está considerado por todos los estudiosos en la materia como el padre ideológico del estado islámico y no solo ideológico ya que nadie duda

y aquellos grupos que se autodenominaron el ejercito libre sirio grupos vinculados con al qaeda

y psoe han mantenido cuando han estado en el poder y mantienen a día de hoy relaciones preferentes con arabia saudí y con sus aliados ustedes les venden

a ustedes y a quien ostenta la jefatura del estado español ustedes tienen como socio preferente al financiador del terrorismo internacional al igual que francia inglaterra estados unidos y todos los gobiernos y gobernantes hipócritas occidentales ustedes alimentan la bestia

y ante la que nadie está preparado porque no hay manera de confrontarlo salvo desde la pérdida de libertades en pos de la seguridad crean miedo pero no dejan de dar de comer a la bestia y es que esa bestia tiene mucho dinero verdad

ustedes detienen a personas por sus relaciones políticas con el pkk detienen a quienes luchan contra el isis y por el contrario defienden los intereses del estado criminal de turquía

ustedes ponen como asesor de contraterrorismo a un alumno aventajado del general galindo ejemplo para algunos de lo que es la defensa de las libertades

pero mientras tanto ni se les pasa por la cabeza acabar con sus relaciones preferentes y dejar de vender armas al estado terrorista de arabia saudí o a sus países aliados como qatar luego les sorprende cuando armas vendidas por los gobiernos occidentales

contra el pueblo trabajador ingles francés tunecino o español

de miles de problemas las políticas sociales en europa ayudarían a no crear guetos en las ciudades la integración y no la exclusión ayudaría a eliminar

a acabar con el yihadismo el fin de los derrocamientos de gobiernos laicos en la región de oriente medio ayudaría el fin de los expolios y de las ocupaciones militares ayudaría el fin de jugar a ser dioses en un tablero geoestratégico financiando grupos islamistas radicales ayudaría

también ayudaría el fin de la venta de armas a dichos estados ayudaría y mucho el fin de las relaciones políticas y económicas con arabia saudí sería clave pero ustedes prefieren limitar la libertad en el estado y en toda europa pero seguir haciéndose fotos con los jeques

y las madrasas de los radicales ustedes no quieren soluciones ustedes nos quieren asustados y temerosos de un enemigo que en realidad ustedes

pues no el denominado pacto ajuria enea era el acuerdo de pacificación y normalización de euskadi y ni siquiera advierten ustedes que citan el pacto contra el terrorismo el acuerdo contra el terrorismo

de diciembre del dos mil cuando nos dedican el preámbulo a eusko alkartasuna y al partido nacionalista vasco

y nos dicen exactamente por dónde debe caminar nuestro pensamiento político y por dónde

alguna dificultad observaciones o una posición contraria niretzako inportantea da guzti hori

el centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado zergatik ez dago ertzaintza alderdi popularrak esan duelako ezetz ez duela egon behar

y medio minuto para decir que una vez más la intervención ha sido vergonzosa vergonzosa para no condenar el terrorismo de eta ustedes han aludido a la sempiterna teoría del conflicto para no condenar el terrorismo yihadista

del mundo árabe pero cuál es la conclusión que ustedes ni condenan el terrorismo de eta ni condenan el terrorismo yihadista

a los familiares de las ciento treinta víctimas de parís a ver si las entiende realmente decía

yo creo que sí es útil porque siempre es útil combatir el terrorismo y usted decía

es como la sociedad vasca ha conseguido acabar con el terrorismo con tesón con no bajar nunca la guardia con no bajar nunca los brazos y llama la atención que parece que usted

porque ha dedicado más tiempo a criticar la oportunidad de la presentación de mi iniciativa

a favor de la unidad de los demócratas contra el terrorismo que a criticar aquellos que quieren ponerse de perfil y que parece que no ven tan claro esa unidad

en esta cámara pero es que da igual en esta cámara no se pudo consensuar una condena cosa que en otras cámara si se hizo aquí tardamos once días y al final hubo una declaración de la presidenta

incapaces y creo que en cualquier ocasión es bueno condenar el terrorismo es bueno poner sobre la mesa la defensa

y la defensa de los valores democráticos siempre lo que pasa es que usted llama la atención como le decía su cambio de actitud

de estrategia pues mire en ese cambio de actitud sí que hay estrategia y eso no es serio señor pastor eso no es serio quizás porque ahora ustedes están intentando llegar a un acuerdo

que no están a favor de ese pacto antiyihadista pues ustedes ya les interesa más no ser tan contundentes

sí es estrategia y desde luego como le digo lo que no es es serio y con relación al partido nacionalista vasco bueno es que las escusas de siempre de verdad mire si me lo he leído si es que lo tengo aquí si es que lo tengo aquí y usted habla de que el pacto

en el segundo párrafo en el segundo el combate contra el terrorismo es por encima de todo el combate

ya se menciona en el primer punto del acuerdo

este parlamento rechaza la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose en euskadi oiga si no era para ir contra el terrorismo y es más después conmina se lo podía leer entero a que sea el gobierno vasco el que se ponga a la cabeza en esa acción contra el terrorismo durante mucho tiempo ahora si usted ahora le quiere dar otra interpretación es muy libre de hacerlo escusas

con relación a la ertzaintza es que no está la ertzaintza

va la policía nacional y después hay un órgano en el ministerio del interior

no accede a la información porque accede directamente la policía nacional que es de quien después se la da a los demás y tampoco me ponga como escusa verdad el tema de la prisión porque le diré qué es lo que pone exactamente pues exactamente usted qué me está diciendo que no le pongamos penas porque como se van a suicidar pues entonces

no o sea es que eso es lo que ha dicho es que es así de kafkiano señor egibar

lo que pone en el segundo punto es que le será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el código penal y qué me quiere decir usted ahora

para el partido nacionalista vasco los terroristas no tienen que tener la máxima pena recogida en el código penal que el delito de terrorismo no tiene que tener la máxima porque aquí no pone prisión permanente revisable no dice la máxima pena que en ese momento esté

que para el partido nacionalista vasco al terrorismo

que no es un delito de suficiente gravedad para eso cuando es un delito que trata de minar las bases de la democracia y le diré que ya tenía más cosas pero no me da tiempo

pues claro que claro que muchas veces en pos de garantizar la seguridad totalmente atacada no por enemigos imaginarios uno tiene

y nos lo dice a nosotros que durante muchos años muchos años

por ser suave diré que he observado cierta

y de eh bildu es decir no han dicho toda la verdad de lo que piensan

antiyihadista es decir no han dicho toda la verdad y lo que básicamente han hecho ha sido utilizar

también para tapar sus propias vergüenzas en relación a esta cuestión vamos a ver una cosa es decir que efectivamente el pacto antiyihadista no puede convertirse en una simple foto cosa que nosotros compartimos una cosa es decir que el pacto antiyihadista es perceptible y puede mejorarse una cosa es decir que el pacto antiyihadista no incorpora una serie de

hacer pero otra cosa es digamos no plantear ningún tipo de alternativa y únicamente ver los puntos que no comparten de ese pacto antiyihadista nosotros lo hemos explicado perfectamente ese pacto es perceptible se puede mejorar

presupuestos medios materiales y humanos etcétera

humanos actuar en el terreno mejorar todo lo posible la democracia efectivamente todo eso hay que hacer pero creo que este pacto antiyihadista es una acuerdo

democrático a día de hoy debería salir cualquier partido democrático debería entrar y me ha dado la sensación en el caso del partido nacionalista vasco que ha utilizado simples para no explicar su verdadera posición porque si no lo que tiene que hacer el partido nacionalista vasco

explicar en concreto qué es lo que haría el partido nacionalista vasco para al terrorismo yihadista que explique cuáles serian las medidas que

ya sabemos cuál ha sido la aportación contra el terrorismo de eh bildu en

en contra del terrorismo de eta durante largos años su aportación ha sido apoyarlo en el caso de ustedes cuál es su estrategia cuáles son sus medidas para incorporar a ese pacto antiyihadista porque efectivamente se ha hablado de la prisión

existe en cuanto está recogido en el código penal en cuanto se modifique ese código penal desaparece

decir a los terroristas se les aplicará la máxima pena recogida en el código penal por lo tanto esta es una excusa como excusa también es

subordinada es una excusa esto no puede justificar que un partido democrático no se incorpore a ese pacto

medidas concretas que puedan ir en la línea de lo que nosotros planteábamos hacer todo lo posible no solamente para condenar este terrorismo sino

pero el partido nacionalista vasco ya digo que no ha planteado ninguna medida concreta y en el caso de eh bildu ya digo aparte del relato histórico que nos ha realizado

de todos los errores que efectivamente se han cometido durante décadas en esa zona eso es cierto hombre habrá que plantear alguna medida concreta para hacer frente a ese terrorismo

y en el medio plazo o cuál es su alternativa corregir la historia corregir todos los errores que se han cometido se puede hacer efectivamente pero además de eso

algo más sin embargo eh bildu en fin se queda fuera voluntariamente también porque es coherente en relación a su pasado reciente y suposición

al terrorismo de eta por lo tanto en fin altura de miras más allá de que podamos ser críticos con algunos puntos

haber sido utilizado en algún momento como una simple foto propagandística yo creo que la obligación

es incorporarse a él y hacer las aportaciones que cada uno considere para perfeccionarlo el terrorismo yihadista nos incumbe a todos no es un tema menor

nuestros propios valores nuestra propia democracia nuestra legalidad vigente y hacerlo por supuesto con todas las garantías y con el máximo respeto a los derechos humanos

nuestra posición como partido político democrático hay que sumarse a ese pacto y tratar evidentemente de perfeccionarlo pero no valen excusas

sí con su permiso desde el escaño no tenía intención de intervenir porque creo que todo lo que había que decir ya estaba dicho

contestar determinadas afirmaciones de la señora llanos por inconsecuentes y por injustas yo no hubiera hecho hoy la intervención que he hecho

todo un ministro del gobierno de españa usó un tema

para ir a examinar a exacerbar a escenificar diferencias respecto a esa política de estado con todas las cancillerías europeas eso es una sinvergonzada

y eso es por desgracia que nos vuelve a traer a la memoria lo indigno con lo que ustedes también

nosotros que también sufrimos como ustedes esa falta de libertad tuvimos

de ir en contra de la vida de ir en contra de la libertad de ir en contra de la decencia

eso es lo que no se puede hacer señora llanos cuando se pide unidad cuando se pide responsabilidad cuando se pide sentido de estado después hay que demostrarlo con los hechos y ustedes

han hecho justamente lo contrario de lo que es una política de estado por mucho que usted se desgañite después

con ese nombre en sus labios porque suena a sarcasmo después de ver

hace escasamente veinticuatro horas y sí quería terminar haciéndole un ruego al partido nacionalista vasco que puesto que comparten una buena parte casi todas las medidas concretas que recoge ese pacto antiyihadista si no es hoy en un día lo más cercano posible reconsideren ustedes su postura

sobre un problema que nos afecta a todos también a los vascos eskerrik asko pastor jauna

vamos a hablar de un tema concreto podamos hablar de ese tema y no

con dicho tema en este caso íbamos a hablar del yihadismo

aquí la persona que les está hablando no han dicho absolutamente nada

causas que han señalado son policiales pero es que las consecuencias es decir cómo acabar con el problema también son todas policiales al menos nosotros sí hemos dado una serie de claves que luego se las repito por si no las han tenido antes

para cual creemos nosotros y nosotras que son las soluciones evidentemente que está en contra del yihadismo pero también estamos en contra de ese pacto pseudofascista que ustedes han presentado evidentemente pero es que si eso no lo digo yo es que lo que está sucediendo

enmienda de transacción sale hoy mismo

advirtiendo que viene tiempos duros para los derechos humanos en europa

se han convertido en medidas permanentes y no solo eso sino que dice tal cual y se lo leo las situaciones de excepción tienen resultados limitados es decir todas sus políticas los resultados que tiene son absolutamente limitados pero los ataques a los derechos son grandes y permanentes la crítica que les hemos hecho aparte de la crítica histórica para contextualizar de dónde viene

supuesto quiénes son los que a nivel internacional son

avanzando y no solo en próximo oriente sino también en europa habría que recordar cuáles son las circunstancias en las que está por ejemplo ahora mismo bosnia pero eso a ustedes les da exactamente igual les da exactamente igual la aparición del islamismo radical no solo en países de la órbita del oriente medio

que un país haya invadido otro país en este caso mali en contra de la legalidad internacional les da exactamente igual luego las consecuencias que pueda tener todo eso y que pueda acarrear

en ningún momento van a las causas es decir por qué no hablan de que uno de los mayores exportadores de terroristas islámicos

son europeos habría que bombardear las ciudades de londres o los guetos de londres y francia para acabar con el isis habría que bombardear a esas personas esa es su solución más policía

cuál es la solución para ustedes no sería una política social de integración

no sería dejarles de comprar petróleo no sería romper las relaciones con turquía que también les compra petróleo al estado islámico mientras tanto ustedes qué hacen todo lo contrario nos dicen que

ni mucho menos ustedes les tendrán que explicar a las víctimas de las que he hablado sus fotos y las de los jefes de estado con los jeques

qatar etcétera dándose la mano y diciendo que son socios preferentes esas son las fotos que tienen que explicar ustedes a las víctimas tenéis que explicar a las víctimas cuando las armas del estado español son vendidas a arabia saudí y esas armas acaban en manos de los

o de cualquier otro grupo radical islamista ustedes tendrán que explicar cómo han llegado esas armas hasta ahí de hecho

en siria se felicitaba y felicitaba al gobierno francés de la venta de armas que este le había realizado y que ya le habían llegado le felicitaba al nusra que es

fueron parte de los que luego asesinaron en parís

nos traen un debate que es simplemente un debate en contra de la libertad

ustedes lo único que quieren es meternos miedo a la sociedad para que gastemos más en armas tengamos menos derecho y para que no les podamos debatir absolutamente nada nos quieren callados pero no nos van a tener callados

ustedes todos ustedes el yihadismo internacional dejen de darles dinero dejen de comprarles petróleo y ahí tendrán una de las soluciones

un poco más voy a hacer uso de la intervención

pastor pero el alegato que hacía solicitando respeto a la posición política desde luego sirve también para medir y considerar políticamente lo que en el pasado

con la lucha antiterrorista cómo se ha utilizado políticamente y partidistamente esa lucha antiterrorista hoy hay uncambio hay una invitación

con el tema de la lucha antiterrorista cuando ustedes dos pp y psoe estando de acuerdo

diferían en algo y empezaba una lucha encarnizada entre ustedes

se ponían siempre de acuerdo y el pacto antiterrorista de diciembre del dos mil es un

es un pacto político políticos y léaselo y el pacto de

de pacificación y normalización tiene un desarrollo un desarrollo político

se habla del contencioso político y del conflicto político que es un pacto de normalización política y de pacificación el de ajuria enea

pero eso no le da a usted pábulo para decir al resto de espectro político que hay que comulgar con la idea que el partido popular tiene sobre esta materia

una mesa de consenso por lo tanto nos vamos aclarando

en cuestión la posición política del hoy candidato a la presidencia del gobierno que está articulando su nueva mayoría

se resiente porque es un cuestionamiento ante todas las cancillerías de europa y el partido nacionalista vasco tiene o puede decir algo

en el pasado el cuestionamiento de la posición del partido nacionalista vasco a favor de todos los derechos humanos y en contra de la violencia y el terrorismo pues tenemos capítulos y capítulos para desarrollar

por lo tanto y para terminar vuelvo a reiterar que más allá de las confianzas o desconfianzas políticas si el gobierno español

también pueda trabajar en la lucha contra el terrorismo yihadista

al ertzaintza como política integral y que pueda tener

al centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado que es una institución nueva a la que puede en la que puede participar perfectamente y que pueda tener acceso a la información

que pueda acceder directamente por qué no accede porque el partido popular el gobierno español

los textos son textos pero léanse los preámbulos de los acuerdos o supuestos acuerdos antiyihadistas que descansa en otro preámbulo

de diciembre del dos mil donde en el preámbulo se fija el objetivo político y es partido nacionalista vasco y eusko alkartasuna y se habla también de la lucha contra el terrorismo

léaselo una política penitenciaria concebida como una lucha contra terrorista de persecución eso está escrito

presidenta es difícilmente separable la crisis económica y sus efectos

de abusos bancarios y financieros que miles de ciudadanos han tenido que sufrir durante los últimos años sin embargo no hay mal que por bien no venga y es posible que

hemos podido ser conscientes y tomar conciencia de los abusos que durante años hemos tenido que soportar la compra o la venta de participaciones preferentes la adquisición o la venta de aportaciones financieras subordinadas

cláusulas suelo las comisiones abusivas la firma de intereses de demora cercanos al veinte por ciento en los contratos de prestamos hipotecarios suscritos la contratación de prestamos hipotecados referenciados al irph

un cúmulo de abusos que se han venido alargando en el tiempo y que han perjudicado a miles de ciudadanos en fin productos tóxicos

o fraudulentas prácticas abusivas que siempre eran justificadas por los perpetradores de los abusos

los ciudadanos se comportaron de manera estoica durante años hasta que la crisis económica sacó a flote todas estas prácticas insoportables y hasta que a los ciudadanos se les acabaron los recursos económicos o les echaron de sus casas y como consecuencia de todo ello se les acabó la paciencia

a semejantes abusos ya en su momento nuestro ararteko denunció tales prácticas y reclamó que se protegiera a los usuarios ante los servicios financieros como consecuencia de la profunda crisis económica decía que atraviesa nuestra sociedad se están evidenciando situaciones de vulnerabilidad y desprotección

y servicios bancarios así como de prácticas bancarias que están provocando efectos no controlados y de gran incidencia en la vida familiar obviamente añadimos nosotros efectos no controlados porque el poder político no controlarlos en demasiadas ocasiones el poder político ha estado amedrentado y subordinado a los poderes económicos o financieros lo sigue estando

o al menos intentarlo los perpetradores de semejantes abusos juegan con ventaja porque saben que manejan los hilos del cotarro pero

este deporte de riesgo que se llama denunciar también las injusticias que provocan la banca y determinados poderes económicos y financieros recientemente el tribunal supremo ha anulado otra tanda de cláusulas abusivas de los bancos

los casos de vencimiento anticipado de prestamos hipotecarios que facultaban a la entidad a exigir anticipadamente la devolución de la totalidad del prestamo si se producía el impago de una parte de cualquiera de las cuotas otras cláusulas consideradas nulas son las que imponen al consumidor el pago de los gastos preprocesales

contratados por el banco cuando el consumidor incumple un pago es decir que es nula ya la obligación automática del consumidor de pagar al banco la actuación que pone en marcha en su contra también se anulan las cláusulas que impiden al consumidor variar el destino del inmueble sin autorización expresa del banco igualmente se declaran abusivas las cláusulas que equiparan la aceptación por parte del cliente

y a la asunción de las condiciones particulares del contrato decenas de abusos que hemos tenido que han tenido que soportar miles de ciudadanos durante

a día de hoy y evidentemente la política tiene mucho que decir en relación también al asunto que hoy debatimos el irph desaparecidos el irph cajas e irph

hipotecarios sin embargo los datos aportados por las entidades no se publican por tanto su determinación es opaca y poco transparente

de esos datos y no representa la realidad del mercado hipotecario español habida cuenta de que al determinarse a través de la media simple de los intereses aplicados por las

todas ellas influyen con el mismo peso específico el irph es influenciable por las entidades ya que al determinarse a través de esa media

de los intereses que apliquen a sus nuevos clientes el correspondiente mes es decir la determinación del irph no está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda

del euribor en grave perjuicio de los consumidores llevándoles en muchos casos a gravísimas situaciones económicas o incluso a la pérdida de la vivienda

abusiva e inaceptable que nosotros queremos no solamente denunciar sino tratar de corregir a través de esta moción que se debate hoy en este parlamento el veintisiete de junio de dos mil trece este parlamento solicitó a las autoridades estatales una pronta desaparición de las variedades irph cajas y bancos cuestión hoy ya cerrada así como el establecimiento del euribor más uno por ciento como índice sustitutivo solicitud que no fue atendida además se instó a las entidades bancarias con índices alternativos en sus prestamos a realizar

por el índice alternativo esta solicitud no fue atendida por ninguna entidad hoy insistimos en defender lo que consideramos que es justo a través de esta moción a través de esta pnl que registramos y que hoy y de ahí las propuestas que nosotros seguimos defendiendo tal y como se registró en su momento original el parlamento vasco declara que el tipo de interés irph es opaco influenciable por las entidades bancarias

claramente perjudicial para los consumidores y que debe ser considerado abusivo queremos que este parlamento diga que este índice es claramente abusivo

y digan hoy aquí ahora que efectivamente ese índice es claramente injusto y por lo tanto abusivo y que tiene que ser por lo tanto derogado queremos pedir que este parlamento inste a las autoridades estatales competentes a decretar su derogación inmediata como tipo oficial de referencia para prestamos hipotecarios queremos que este parlamento inste a las entidades bancarias que lo hayan aplicado

y a reintegrar a las personas consumidoras todos los intereses cobrados en referencia a dicho índice queremos que este parlamento inste a las entidades bancarias a devolver las viviendas desahuciadas por ejecución de hipotecas referidas a cualquiera de las variedades de irph queremos que este parlamento inste al gobierno a poner en marcha todos los medios a su alcance incluyendo kontsumobide

por este índice y para la protección de futuros firmantes de prestamos hipotecarios y que este parlamento inste al parlamento europeo al consejo europeo y a la comisión europea

sea aplicable también a los tipos de referencia que como el irph son elaborados por los bancos centrales esta es nuestra propuesta y finalmente hemos decidido mantenerla en su texto original la propuesta evidentemente de la plataforma de afectados únicamente

presentó enmienda el grupo nacionalistas vascos en los últimos días o en las últimas horas ha tratado de acordar una enmienda de transacción con upyd se lo agradecemos creo que ha sido generoso en sus planteamientos pero nosotros hemos decidido mantener el texto original creo que no caben rebajas creo que no caben

creo que la moción la pnl tiene que mantenerse tal y como está bastante se ha sufrido ya bastantes injusticias se han cometido bastantes abusos han tenido que sufrir

en el último momento decir que efectivamente aceptamos rebajar las exigencias de este texto original es un texto contundente exigente pero creo que es justo y sería un motivo de alegría que esta iniciativa fuera

de grupos gracias por lo tanto al grupo nacionalista vasco por su generosidad en relación a la propuesta de esa enmienda de transacción de hecho su enmienda

aceptados sin embargo suponía también una rebaja en relación a nuestras exigencias iniciales y como digo no es momento de cesiones no es momento de rebajas es momento de denunciar todas las injusticias y todos los abusos que se han cometido durante largos años

el poder político está subordinado a los poderes económicos y financieros hablamos de debates como el de ahora mismo se trata de que el poder político diga y expresamente diga público públicamente que esto que se ha hecho

no puede haber más ciudadanos afectados y todos los ciudadanos que han sufrido tengan que ser efectivamente bien tratados y repuestos en sus derechos nada más y gracias

muchas gracias señora presidenta yo creo que el señor maneiro ha desaprovechado la oportunidad de

un debate sobre esta cuestión cuando menos con cierta seriedad porque es verdad que hay muchas sentencias del tribunal supremo declarando cláusulas abusivas muchas cláusulas de todo tipo de contratos de los bancos pero no es menos verdad

porque es que la audiencia provincial de gipuzkoa ha revocado todas las sentencias que decían lo que usted dice aquí por eso estamos aquí hoy

pero por eso estamos aquí hoy si no no estaríamos hoy aquí debatiendo esto por lo tanto

lo que usted nos trae aquí es que nosotros digamos lo que la audiencia provincial de gipuzkoa ha dicho que no es así

opaco influenciable por entidades bancarias no representativo de la realidad del mercado y yo creo que

y hay que saber qué es el euribor y qué es el índice de referencia de prestamos hipotecarios o irph

el euribor que por cierto nadie lo tiene

del precio que tengan pactado es un precio de mayorista que este sí que lo fijan los bancos lo fijan los bancos en provisión de ingresos ciertos bancos europeos en previsión digamos de los tipos

van a tener así se fija el euribor precio mayorista para los bancos minoristas por eso los bancos

cada uno el suyo cuando usted dice euribor más uno tiene que ser obligatorio pues a los mejor el banco es que con el euribor más uno pierde el dinero y no darán prestamos hipotecarios

literalmente y cuando usted dice el irph es manipulable los bancos lo manipulan hombre vamos a ver una cosa era

cajas que ya lo derogó el gobierno

que una caja pequeñita sí podía influir en el tipo medio y otra cosa es el que tenemos hoy en día y ojo se fija cómo con los tipos

la media de los tipos reales hipotecarios que todas las entidades bancarias de españa sí que todas las entidades bancarias de españa aplican y usted me dice es opaco

no comprueba si esos son los tipos de verdad hombre los tipos hipotecarios que yo sepa van al registro de la propiedad en garantía de la hipoteca

es que según usted el banco de españa está incumpliendo esas obligaciones que tendría que tener pues lo lógico es pedir que el banco de españa haga más o haga un no sé qué que es lo que según usted no hace lo suficientemente

y que todo el mundo lo sepa porque el euribor hoy está muy bajo el euribor puede ser negativo

pagándole a la gente por prestarles dinero por una hipoteca

me apunto hacemos el debate real

reales o no no me vale que se diga que la audiencia provincial de gipuzkoa

las resoluciones de algunos juzgados de primera instancia cuando esa misma audiencia sí que ha condenado a kutxabank precisamente

como tipo sustituto por otro en la renegociación del contrato por lo tanto parece que en fin los señores jueces de la audiencia provincial de gipuzkoa

en fin incumple la normativa pues cogen y lo aplican cogen y lo aplican

con que el tipo de referencia se fije por el tipo medio de referencia

pues habrá que buscar otro tipo de referencia pero yo que quiere que le diga yo casi me niego más a que el de referencia sea el euribor que depende de una reunión de una serie de bancos en europa que deciden si sube o baja en función de otras cosas

y no de la realidad del mercado tampoco me parece que el irph actual

sea tan alto yo recuerdo que yo empecé a pagar mi hipoteca al diecisiete por ciento

en fin si queremos hacer un debate serio sobre este tema me parece bien

o lo que ha intentado decir el caso cierto es que a día de hoy no hay ninguna sentencia firme que diga lo que usted ha dicho

influenciable por entidades bancarias influenciable oiga si usted firmar un prestamo hipotecario al dieciocho por ciento hoy si usted acepta firmar eso pues claro que será influenciable porque claro va usted a subirnos la media a todos pero tampoco creo que haya mucha gente dispuesta a hacer esas cosas

que podían tener antes las cajas pero en fin hay cierta competencia hay cierta competencia yo también le diré en fin a mí lo de las cajas yo nunca he tenido he procurado no ir a las cajas porque siempre ha sido el tipo más alto siempre ha sido el tipo más alto

pues supongo que tendrían otros beneficios peor me parece a mí cuando te obligan

con esa misma entidad para garantizar el pago de la hipoteca que me cuesta más por qué lo tengo que hacer con el banco o con la caja y no puedo ir donde una entidad de seguros

si eso me puede costar más que el diferencial de tipos de medio punto

de zero koma bi y yo creo que ese es el debate que teníamos que tener no el decir que el irph

y cuando el euribor suba entonces va a ser injusto el euribor porque sube porque baja pues esto no es así

la vida no funciona así a nosotros nos gustaba más

yo hoy no soy capaz de decir cuál es la mejor fórmula o la que mejor garantiza que el tipo real efectivo medio que queremos tener todos a la hora de ir a pedir una hipoteca sea este o ese

el irph bien llevado me parece que por lo menos es un tipo medio de mercado si hay mercado de verdad y si hay competencia de verdad con la cajas era más complicado que hubiera esa competencia de verdad hoy ya no hay cajas

y todos compiten por dar hipotecas y es evidente que esa competencia significa que bajan los tipos por eso están hoy a los precios que están y no a los que estaban pero todos ellos y en cualquier caso pues bueno si se va a poder votar por puntos pues votaremos

en la propuesta inicial que se nos trae pero en cualquier caso también le digo estamos aquí hoy con este tema porque la audiencia de gipuzkoa

sentencias es decir por lo tanto esto de que es opaco injusto ilegal y todo lo demás pues precisamente hoy lo que está acreditado judicialmente es lo contrario es lo que está vigente salvo que el tribunal supremo en su momento

este asunto se ha debatido en ocasiones anteriores en esta cámara de manera que nosotros damos por reproducidas las manifestaciones

momentos y en consonancia con esas posiciones votaremos a favor de la iniciativa presentada nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna

es una iniciativa original creo que no habría ningún tipo de problema puesto que los grupos que han pedido la votación por puntos serían favorables a votar a favor de los puntos

creo que no es mala opción dar opción a estos grupos a apoyar algunas de las iniciativas planteadas algunos de los puntos

iniciativa tampoco parece que sea tan revolucionaria

ni el partido popular ni el partido nacionalista vasco van a votar en contra de ninguno de los puntos por lo tanto creo que llegamos a la conclusión de que es una iniciativa perfectamente razonable y

resolver una injusticia y trata de señalar una injusticia cometida durante

no habría problema por lo tanto para que ustedes puedan votar por puntos vamos a ver

que haya determinado definitivamente que este irph sea opaco influenciable no representativo del mercado hipotecario

tampoco hay ninguna sentencia que diga que no lo sea en el momento en que hubiera una sentencia que dijera todo esto creo que este parlamento y la posición de este parlamento incluso podría hasta sobrar salvo para exigir las responsabilidades políticas a los responsables

se trata de que el poder político esté por delante y a la vista de como funciona este irph a la vista de la comparecencia

que se produjo en este parlamento hace algunas semanas a la vista de todos los argumentos que hemos podido ir estudiando

política es que efectivamente este índice es opaco influenciable no representa hipotecario español no está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y porlo tanto es abusivo digamos que es un planteamiento político una vez analizado a fondo cómo funciona cómo ha venido funcionando este índice creo que sería interesante

especialmente aquellos portavoces que no estuvieron en aquella comparecencia

que pudieron releer los argumentos del

explicó perfectamente bien cómo funciona

debíamos presentar esta iniciativa nosotros estudiamos el asunto

decidimos registrar esta iniciativa efectivamente

de totalidad que yo entiendo es una rebaja en relación a las reivindicaciones

y así se me ha dicho además por parte de esa plataforma sin ir más lejos en relación a la devolución

desahuciadas y algún otro punto adicional más allá de que algunos de los puntos que ustedes deciden aportar con esa enmienda pudiera ser razonable también pero creo que en general en general lo que hace es enmendar una propuesta

y en ese sentido nosotros consideramos que rebaja las exigencias iniciales

las exigencias iniciales por otro lado el señor damborenea ha venido a decir lo que ha dicho en otros debates relativos a este tipo de cuestiones no aquello de en fin la gente ya sabía lo que firmaba

a día de hoy sinceramente decir tal cosa es un insulto a miles de ciudadanos que han sido estafados por la banca y por la forma que ha tenido la banca y las cajas de comportarse

abusos y podemos hablar de las aportaciones financieras subordinadas de las preferentes de las cláusulas suelo miles de ciudadanos miles de ciudadanos que efectivamente fueron engañados o que no recibieron la información suficiente por lo tanto creo que esa afirmación

creo que sobre todo no es justa no es justa y creo que debería desterrarse ese tipo de afirmaciones se han producido muchos abusos

comportarse y que únicamente la crisis económica y la conciencia de muchos miles de ciudadanos han hecho posible que estos asuntos se pongan encima de la mesa

en fin ya digo cláusulas abusivas comisiones exageradas preferentes o aportaciones financieras subordinadas creo que no es justo

desde la política de más allá de lo que puedan decir los tribunales en relación a que a si este es un índice ilegal no hemos dicho que sea ilegal sino

y decirlo nosotros mismos en base a los datos de los que ya disponemos y habiendo conocido las injusticias que miles de ciudadanos han padecido en los últimos años amaitzen joan maneiro jauna sería interesante que esta iniciativa pudiera salir en fin por lo menos

en contra creo que haríamos justicia y haríamos mucho bien a la dignidad de los parlamentarios de esta cámara eskerrik asko maneiro jauna

señor maneiro lo que le he dicho no es que no haya ninguna sentencia que no hay ninguna firme no hay ninguna firme

y en la audiencia están recurridas al supremo por lo tanto lo que no hay es ninguna sentencia que diga ni si es injusto si no es injusto hombre yo no he dicho que la gente ya sabía lo que firmaba no sea usted injusto porque yo no he dicho eso ahora nadie sabe en este país qué firma no no nadie sabe usted tampoco no aquí vamos a ser claros y yo debo ser de los más tontos

por la mía pero yo sí que no sé

que deje de hacer demagogia porque las cosas no son así este es un tema serio a mí no me gusta pagar más dinero del que debería no sé si a usted le gusta

a mí no supongo que a nadie le gusta pagar más verdad ahora también le diré una cosa es estamos hablando de prestamos hipotecarios no estamos hablando de otros productos

va desfilando por una serie de bancos todos los que conozco lo hacen

tipo el plazo y al mes cuánto me sale esas tres cosas

y luego te encuentras con lo que le he dicho a usted cuando ya he decidido me dice pero ahora tienes que firmar el seguro este de vida y ese sí que no ha sido

haber si tengo otro más barato porque o lo firmas ahí en ese momento

porque no es una cláusula de la hipoteca entonces cuando le estoy diciendo en fin habrá a quien sí a quién le han engañado se lo he dicho a usted claro que le han engañado en el banco kutxabank

guipuzcoana que tenía

y cuando va a renegociar se lo quitan sabiendo que el irph cajas desaparecía

que era más alto que era más alto pero cuando firmó inicialmente

le repito que debo ser de los más tontos de los que menos leen y al que más engañan

pero no voy por ahí diciendo que no sabía qué tipo estaba firmando

no sé si me entiende y en cualquier caso pues mire le agradezco que nos permita votar por puntos no vamos a votar a favor de ninguno pero si entre todos decidimos que se suprima

pues habrá que inventarse alguno o lo dejamos a los bancos que decidan sin ningún tipo de referencia porque ese es el planteamiento

bide beretik joan da erantzuna beti azken batean esaten dutena da corresponde en el ámbito privado empresa y trabajadores y trabajadoras

esan zuen es el momento del diálogo de verdad del diálogo y de que el comité de empresa haga su trabajo

dirua itzuli beharko luketela estamos convencidas de que el modelo actual de relación

ha fracasado cuántas empresas como he dicho anteriormente han recibido dinero público en algunos casos muchos dinero incluso desde su nacimiento y han acabado

deslocalizando y dejando a los trabajadores y trabajadoras en la calle pues creo que muchas esto es lo que creemos que hay que cambiar y que las instituciones

situación vamos a ver si tenemos voluntad cómo podemos y debemos hacerlo decíamos en aquel pleno y lo recordamos hoy

de recuperación de ayudas públicas por lo menos en el supuesto de deslocalizaciones empresariales dicha

creemos que es un paso creemos que hay que dar más y que este parlamento tiene que dar algún paso más

la deslocalización lograr el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales y favorecer e incentivar la vinculación territorial en aquellas empresas susceptibles de trasladar sus plantas o su producción a otros lugares

de aquellas ayudas públicas y subvenciones hemen aipatzen du que no se realicen con cargos a fondos de la unión europea planteatzen ari gara jaurlaritzak

a debate hoy surge por el episodio que tuvo lugar con el propósito de llevar a cabo un ere por la empresa aernnova

de carácter general para proteger digamos el empleo para evitar la deslocalización y por lo tanto el debate se centraría sobre todo en qué medidas

a mi modo de ver sí deja algunas reflexiones que aún sin conclusiones me permito poner de relieve la primera de ellas es que

con mucha insistencia en los últimos tiempos sobre que el empleo de calidad se basa precisamente en la innovación en el desarrollo

que es paradigmática en este tipo de elementos pues ya planteaba una destrucción de empleo por lo tanto

por lo menos en cuestionamiento otra reflexión también que me surge de pasada sobre este tema es

crezcan en tamaño sin duda eso puede ser beneficioso pero no sé si para la parte social también para la parte económica seguro pero claro cuando las empresas crecen en tamaño se ven obligadas a competir con otras de su mismo rango

la deslocalización que es en lo que voy a entra ahora directamente es un modelo que termina por imitarse termina por competirse con él y entonces vemos que la deslocalización es un fenómeno no local no ocurre solo aquí sino que es un fenómeno universal y extendido en todas partes las razones y las causas por las que se produce pueden ser múltiples pero en definitiva

o a unas condiciones laborales que constituyan mayor beneficio para las empresas claro en esta situación

siempre van a tratar lógicamente de proteger su tejido de tratar de mantenerlo pero efectivamente este fenómeno escapa con facilidad

de mantenerlas y en esto que llamamos la globalización la trashumancia de las empresas sobre todo de naturaleza multinacional pues es más que evidente

a esto claro hay que añadir también pues eso que europa entiendo yo que no tiene tampoco una política industrial muy definida españa

y claro añadido a todo esto la falta de armonización fiscal la competencia entre regiones para

un problema que no es de fácil solución claro euskal herria bildu

como corresponde a su cultura política en términos de que una propuesta normativa terminaría por zanjar y resolver este asunto si así fuera

y no parece que esa haya sido solución o fórmula que haya resuelto los problemas

y sin hacer mucho hincapié porque nosotros no hacemos tanto hincapié en el tema de las ayudas las ayudas

responden digamos a políticas que desde los gobiernos se tratan de auspiciar

decisiones futuras pero no es menos cierto también que hay empresas que

de conveniencia precisamente al calor de ayudas que pueden surgir de abaratamiento de costes y demás para luego en el momento en el que encuentren ubicaciones más competitivas dejar compuesto y sin novio

por eso nos permitíamos plantear que en lo que es la regulación de subvenciones y ayudas se considerará

aquellas ayudas que se puedan otorgar merecidamente sí pero con el compromiso en fin de que efectivamente esas empresas se mantengan en el lugar si las empresas tienen como opción futura la estrategia de poder marcharse en un momento dado pues debieran de evaluar si les merece la pena optar o no a lasayudas porque si en un momento dado la estrategia

les sirve mejor a sus fines a sus intereses económicos bien es una opción que igual no se puede impedir pero por lo menos

en fin provisional mientras tanto decidan no permanecer aquí

que agradezco a euskal herria bildu que haya contemplado en fin como razonablepara suscribirla nos habría gustado ciertamente que el acuerdo fuera más extenso y que concerniera a más grupos de esta cámara señaladamente al partido nacionalista que tenía también enmienda no ha sido posible porque seguramente este debate

complejidad que lo que aquí podamos debatir en este tiempo breve verdad sin embargo creemos señor telleria que en fin que la propuesta que suscribimos euskal herria bildu y el grupo socialista

texto refundido de principios ordenadores de la hacienda vasca se contempla efectivamente con carácter general cómo se rige el sistema de ayudas y subvenciones y se plantea que efectivamente en el artículo cuarenta y nueve punto cinco

anual de la comunidad autónoma se procederá a actualizar y revisar en su caso o establecer normas reguladoras de la concesión de las subvenciones de los programas y realizar la convocatoria correspondiente es decir

de la normativa reguladora de la concesión de subvenciones por eso digamos entendíamos que era un momento oportuno para plantear la propuesta de que se considere con carácter reintegrable esas subvenciones si

digamos desaparecer de nuestra geografía esa es la razón por la que hacíamos la propuesta

el resto de los grupos nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria telleria jauna

claro cuando vi la moción

al sistema general a la legislación subvencional general y caí en la cuenta que lo mismo que el pisuerga pasa por valladolid descubrí que por berantevilla pasa le rio ayuda

han sacado la conclusión ayuda berantevilla subvenciones euskadi aunque alguien también puede pensar de otra manera porque por berantevilla también pasa otro rio el rojo

diru publikoa eman laguntzez jasotzeko baldintzak betetzen dituztenei las subvenciones se soportan por una legislación

una serie de requisitos legales que se deben de cumplir independientemente de las cláusulas particulares de cada uno cláusulas que lógicamente depende del interés incentivador de cada uno de los decretos los más generalizado es que los decretos reguladores exijan unos mínimos

como son genéricamente estar al corriente de pagos de hacienda

y en términos generales en el caso de empresas muchas las cuentas auditadas del último año datu hauekin informazio nahikoa izan ohi da

y ahí está el asunto la cuestión la moción presentada por bildu pretende que la política subvencional del gobierno recoja la vinculación territorial de las empresas así como cláusulas sociales así en genérico entre las que solo se solicita mantener condiciones laborales y todo ello porque se hace una lectura concreta y entiendo que subjetiva de la subvención

es que se presenta una moción pareciendo que no se exige nada la propia ue en las directrices sobre ayudas estatales y en el reglamento sobre ayudas compatibles con el mercado interior recoge textual a fin de garantizar que la inversión suponga una contribución efectiva y sostenida al desarrollo de la zona en cuestión

o de tres años en el caso de las pymes punto desde su finalización desde la finalización de la inversión y las ayudas del departamento de desarrollo económico

que son los instrumentos de incentivación de la inversión productiva cumplen a raja tabla la norma como no podía ser en caso de no cumplirse tal requisito se solicita la devolución de la ayuda como ya ha ocurrido en algún caso halaber

y sabido que el gobierno vasco cumple la normativa aplicable en la materia

condiciones que vayan más allá del objeto subvencional y no desde un único caso si lo que se trata es de impulsar inversiones productivas en las empresas deberíamos analizar si el horizonte de tres o cinco años de permanencia tras finalidad la inversión se suficiente o no lo es y por qué

cuánto tiene que ser diez veinte alguien tiene la fórmula para conseguir la vinculación per secula seculorum

alguien la conoce podemos resolver eso vía una ley vía una proposición no de ley vista la transacción no obstante veo que se han echado algo atrás y visto que ya en el euskadi aplicamos la normativa

en cualquier caso movernos del entorno normativo en el que estamos si se utilizan vinculaciones territoriales para cualquier ayuda a cualquier empresa por pequeña que está ayuda sea estaríamos rompiendo las reglas del mercado interior

que el resto de europa se las pone a las suyas a ver si con ese sistema

que no se puede tratar bajo el mismo rasero una ayuda a la inversión para hacer una nave nueva o para comprar toda una maquinaria nueva

que la de dotar de tres becarios a una empresa y en la transacción se trata todas las ayudas bajo el mismo rasero

nuestro problema no una lectura en positivo de la necesidad de que el gobierno haga políticas para conseguir o lograr en la medida que pueda la vinculación no es que se trata todo bajo el mismo rasero cada decreto respeto a las clausulas sociales por cierto a la segunda parte vinculadas a la subvenciones ya les he explicado que se exige el cumplimiento de la legalidad más estricta

pero no hay subvención que pueda exigir legalmente unas condiciones laborales concretas

cada decreto subvencional exigirá que se cumpla lo comprometido en la solicitud y que se cumpla la legalidad vigente entre otra

pero hay tanta pasión por el control público de lo privado

y el de las privadas relaciones entre trabajadores y empresa que por cierto ya están también ellas sujetas a su legalidad diru laguntzak sustapen produktibokoak bederen

creemos que solo con el continuo apoyo al esfuerzo se podrá lograr un tejido empresarial aferrado a un territorio en el que se sientan protegidos ayudados y valorados

lograremos más empleos y de más calidad y no con exigencias que vayan más allá de la legalidad y de lo razonable y coherentemente exigible para lograr los objetivos perseguidos

todo lo cual es positivo para generar empleo y empleo de calidad pero en ningún caso entendemos que la política de subvenciones es un instrumento para interponerse en las relaciones laborales

se ve en definitiva que eh bildu ha terminado por asumir parte de lo ciertamente irracional que era su moción original

renunciando a esa generalidad de cláusulas sociales y es que en definitiva para concluir los cambios que no son suficientes lo han sido porque ellos mismos

por un lado han intentado generalizar desde una lectura subjetiva concreta y por otra sugieren controlar las relaciones privadas desde la cooperación pública contradicción y aunque werber ya dijo que la contradicción es el motor del pensamiento con lo cual podríamos agradecerles

les aclaró que las contradicciones no existen y cada vez que creas enfrentarte a una

que alguna está equivocada pues eso a buscarla muchas gracias eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz

gracias presidenta buenos días señorías vamos a ver vista

inicial que da lugar a este debate creo que podríamos estar todos de acuerdo en la preocupación sobre la situación de los trabajadores del país vasco

vengan a menos para mantenerlas incluso para mejorarlas y el fin me parece positivo incluso viniendo de una interpelación sacando el caso concreto de los trabajadores de aernnova

es una iniciativa de propaganda y no es otra cosa no tiene nada más es decir instar al gobierno a que en dos meses nos presente aquí un proyecto de ley

de dudosa legalidad en alguno de los aspectos que se han comentado hoy en esta tribuna

en el próximo periodo electoral que no ha cumplido con los mandatos del parlamento evidentemente yo no estoy aquí para proteger al gobierno pero eso me parece un juego

una iniciativa espuria que juega con los intereses de los trabajadores en este caso concreto con los de aernnova me parece que tenemos que ser mucho más serios

no existe ningún interés en que se haga la podían haber presentado ustedes directamente si tanto conocen el asunto y tanto les preocupa porque para eso tienen iniciativa parlamentaria pero no nos la traen aquí porque saben que no va a salir adelante por lo complejo

precisamente esas medidas para evitar la deslocalización de las empresas deslocalización de las empresas que se puede deber a muchísimos motivos y que precisamente muchos de ellos pueden ser provocados por la propia inacción del gobierno ya estamos viendo cómo está gestionando este gobierno las políticas activas de empleo

ponerse una medalla no está creando empleo vamos a unos ritmos muy muy lentos y precisamente esa inactividad del gobierno puede generar que en aquellas empresas que se han beneficiado de determinadas líneas de subvención

la empresa no funciona o se tiene que marchar es decir volveríamos a castigar doblemente al empresariado que son los que tienen que crear riqueza

creo que es un asunto sumamente delicado y para analizar punto por punto línea por línea en cada una de las subvenciones o tipos de subvenciones que se nos dan aquí

centrarse unirse al territorio evitar que esas empresas se vayan en el momento en que sean beneficiarios de esas subvenciones otras

meter todo en el mismo paquete y eso es precisamente lo que nos va a echar atrás a la hora de apoyar esa transacción es imposible es imposible no podemos castigar a una empresa que ha creado una serie de puestos de trabajo durante un periodo de tiempo determinado y ha recibido subvenciones para fomentar la igualdad entre los trabajadores entre hombres y mujeres trabajadores de la empresa a

una línea o todas las líneas de producción en otras zonas y además creo que estamos

todo este debate desde un punto de vista muy negativo creo que en el país vasco tenemos los mimbres suficientes para hacer que nuestro territorio sea atractivo

aquí lo que hay que hacer no es castigar a las empresas que vienen a crear puestos de trabajo lo que hay que hacer es un territorio atractivo para que esas empresas vengan

a las subvenciones tenemos que crear un territorio atractivo para que todas las empresas las de aquí y las de fuera vengan y creen riqueza no ponerles trabas

estatal aplicable de nuestra propia legislación emanada de este parlamento y de la legislación europea hay que respetar la libertad ya sé que a ustedes eso no les gusta mucho pero incluso la libertad de los empresarios a la hora de decidir dónde se instalan por qué tiempo

y eso es lo que nos va a permitir generar riqueza que es lo que realmente a la larga va a permitir elevar y mantener las condiciones de todos los trabajadores muchas gracias

yo creo que en la posiciones que aquí se van a mostrar

propositivo que tiene esta enmienda de transacción y voy a detenerme un poco en lo que dice en el punto primero lo que dice es que a fin de combatir la deslocalización que hemos convenido en que es un

que no es de agrado favorecer e incentivar

para evitar la deslocalización alguien de los aquí presentes cree que esto no se hace en ningún lugar favorecer e incentivar el mantenimiento de las empresas en el lugar donde radican y evitar su deslocalizacion

y que incentiven yo creo que se vienen haciendo por lo tanto no veo ningún anatema en todo esto

punto cuando se dice que se trata de salvaguardar los principios de interés público y de gestión eficaz de los recursos económicos hombre creo que esto es una evidencia yo he citado antes los principios ordenadores de la hacienda vasca

la estratificación de dichas ayudas que si son de formación creación de empleo innovación inversión productiva en términos generales y se contempla también la posibilidad de su reintegración cuando no se cumplen requisitos y cuando hablamos de la gestión eficaz de los recursos públicos estamos hablando efectivamente de que si el gobierno otorga ayudas y subvenciones públicas algo tendrá que decir el parlamento

sobre ello y plantear que no se va a poder impedir efectivamente las empresas van a tener esa libertad de moverse de un lado a otro y nadie va a poder impedirlo pero

que se financie formación o se ayude a la formación y esa formación termine digamos redundando en beneficio de otra región o de otro lugar me da igual o la creación de empleo es decir al final los destinos de esas ayudas son

para crear empleo para mantenerlo para progresar y por lo tanto si al final las empresas desaparecen del escenario después de haberse acogido a las ayudas

pero también ocurre que hay iniciativas empresariales que son

y que saben ubicarse allí donde las ayudas son más jugosas pero no con el propósito de estacionarse in illo témpore sino de coger las ayudas y cuando sea preciso moverse por eso señor tellería yo cuando le oía hablar de la defensa de la legalidad de esa manera

yo creo que la legalidad en esta propuesta no está digamos en cuestión lo que se está exhortando al gobierno que entiendo que ya lo hace además

ningún cambio en su cultura pero lo que le exhortamos es a que efectivamente

el mantenimiento de las empresas y del empleo y que no es una medida disuasoria simplemente es que no se puede premiar a quien finalmente en el tiempo en el medio o largo plazo no está pensando efectivamente

corporativa o no está pensando en las necesidades del territorio sino solamente en sus beneficios pero es que cuando hablamos de las empresas hablamos de las empresas como un todo

están constituidas por dos elementos por un binomio antitético capital y trabajo y cuando

claro hay que concretar a qué parte de la empresa le viene bien porque cuando esas medidas constituyen una amenaza por ejemplo a la parte social pues obviamente hay fuerzas políticas que tenemos que intervenir para decir hombre creemos que hay que proteger también a la parte social que no podemos dejar a la merced de estos fenómenos de nuestro tiempo

sin trabajo y descompuesto entonces esto no va a corregir ni mucho menos este fenómeno ya sabemos esto no va a ser suficiente

pero por lo menos no se favorecerán de los recursos públicos de todos para aumentar su saber hacer o mejorar sus sistemas productivos

beneficiando a otros lugares y a otras regiones que puede ser lícito pero entiendo yo que no con nuestros recursos eskerrik asko itxaso jauna

mahaiburu andrea bien creo que voy a ser breve

de que no han leído muy bien los enmendantes en la transaccional ni la normativa general de subvenciones ni se han

todos los decretos subvencionales del departamento de desarrollo económico aunque realmente señora arrondo si usted quiere diferenciar en que

y la propuesta a la enmienda que presentamos nosotros es que los dos avanzamos exactamente lo mismo

hacer lo posible para algo que nos preocupa que es la vinculación territorial no piden que cambien ustedes no piden en la transaccional que cambien nada le dicen al gobierno mire haber cómo lo tiene y dele una pensada

que es lo que nosotros hacemos también hacemos le pedimos una pensada porque en el fondo ustedes no saben bien

porque estamos sometidos a unas normativas que estamos empeñados en nuestro grupo que hay que atender que son las normativas comunitarias

tienen cofinanciación comunitaria casi todas no todas y la preocupación

tanto como ustedes y sino en cualquier caso les invito en el caso concreto que ustedes han sacado de aernnova no recuerdan como salió la consejera de desarrollo económico y competitividad y el diputado general de araba

luego esa es una muestra pública de nuestra preocupación real que siempre

eso es un método extremo seguramente por cierto por cierto solo una curiosidad perdóneme señor itxaso he hablado de las contradicciones de eh bildu usted alguna tiene porque

es la que ustedes y nosotros firmamos y aprobamos en juntas generales de gipuzkoa no se

los pactos son los pactos y los acuerdos son los acuerdos y el psoe de gipuzkoa y el pse de aquí creo que es el mismo pero bueno es más usted

por dejarlo caer y cuidado con las vinculaciones territoriales cuidado

que la normativa del gobierno vasco aplica la de la unión europea y exige la vinculación territorial de las inversiones productivas

cuando las subvenciones para crear empleo lógicamente pero

hay una administración la central de madrid que se ha inventado un sistema para

central nuclear de garoña he repasado múltiples subvenciones

la legislatura pasada las que otorgo la diputación foral de gipuzkoa gobernada por bildu las he repasado

y todo lo que he buscado no he encontrado ninguna referencia a ninguna cláusula social ni a ninguna vinculación territorial

para terminar como dijo buda como flores hermosas con color pero sin aroma
son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellos muchas gracias eskerrik asko telleria jauna

gracias presidenta señora arrondo es que el problema yo creo que ha sido precisamente que del texto que hemos iniciado

a lo que está terminando y a lo que se ha dicho aquí hay un abismo hay un cambio total

por supuesto que sí y de otras muchas empresas pero de ahí a elevarlo a las conclusiones que

pues insisto que la distancia es muy grande e incluso puede saltarse la legalidad por supuesto que hay que controlar dónde va el dinero público pero no para evitar la deslocalización

negocios ficticios que viven solamente amparados de la subvención pública

subvencionales pero lo que ustedes están proponiendo hoy

que han firmado con el partido socialista es que se devuelvan todas las ayudas y subvenciones todas

tenga que total o parcialmente llevarse la producción fuera de la comunidad autónoma del país vasco si se va de araia a alsasua también si se va de oion a logroño también

intereses superiores para tener que mover una parte de la producción

esos genéricos son de imposible cumplimiento y por eso le insisto que me parece que han venido aquí a utilizar o aprovecharse de los derechos de unos trabajadores y la preocupación de unos trabajadores para hacer un discurso electoral un discurso político que realmente está vacío porque

no es de posible cumplimiento cuando nos pidan que controlemos dónde va el dinero de todos los ciudadanos vía esas líneas de subvenciones una a una nos encontrarán pero desde luego en discursos

el parlamento vasco destaca el esfuerzo realizado desde el dos mil nueve por la empresa y el conjunto de los empleados

flexibilidad que han permitido superar todos los problemas que han ido surgiendo durante estos años en este sentido

sobre todos los pasos que vaya a dar para así evitar la incertidumbre en la que viven hoy centenares de familias y toda la comarca de la margen izquierda

y especialmente en zonas desfavorecidas se consiga con la implicación de los agentes sociales institucionales tal y como se está haciendo en la ponencia creado en el parlamento vasco

que se coordine con dichos agentes en todas las actuaciones que lleve adelante para defender el mantenimiento de la actividad

en sestao o en cualquier otra de cualquier empresa en el país vasco horregatik

así como toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual entendemos que la violencia sexista es la expresión más grave

derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres eusko legebiltzarrak